eta edo izaro kantariarena he mencionado artistas de muy diferentes épocas y de diferentes disciplinas y es que queremos que en lo que respecta a sus contenidos esta biblioteca digital nacional vasca parta de un concepto amplio

de disciplinas variadas tanto los contenidos para la lectura como el arte la música o el audiovisual es por tanto casi

y tiene una gran complejidad no se trata de un edificio físico pero igualmente hay que construirlo y lo queremos edificar de manera compartida la fundación sancho el sabio nos va ayudar a construir los cimientos de esta biblioteca digital

también será fundamental contar con la colaboración de las diputaciones forales y de otros agentes de referencia en el mundo de la cultura vasca como son

es también importante fijar con claridad los criterios que deben orientar la elaboración de la bibliografía básica de la cultura vasca que como he dicho en nuestra opinión debe ser ambiciosa abierta y flexible creemos que las obras elegidas para esta bibliografía deben reunir alguna de las siguientes condiciones en primer lugar

dos obras creadas por autores y autoras nacidos o residentes en el país vasco tres

ez den ez duzue zuen hitza bete han actuado sin pudor señor lehendakari pudor que quiere decir honestidad

y la retahíla de escusas que han puesto sobre la mesa ciertamente producen indignación aurrekontu txarrak dira murrizketa gehiago ekarriko dituztelako babes

armada diruz hornituko dituztelako han usado y digo usar

los pensionistas y las pensionistas sin pudor sin importarles que este acuerdo no sea un acuerdo estructural que sea un parche pero mañana podrá ver en las calles de euskal herria a miles de pensionistas que están en contra de ese acuerdo y tratan además de vendernos

inversiones por valor de quinientos millónes de euros señor urkullu dígame por qué este año sí cuando el año pasado

este año sí cuáles son las garantías para que este año podamos decir que esto va a ser así

eta ez onartuko aurrekonturik y han negociado y han votado con el ciento cincuenta y cinco en vigor mientras se impide

oía al señor torra decir que los vascos somos de palabra que confiaba en el pnv habrá que preguntarle

mire españa es el país en el que la receta es la sumisión sea usted sumiso ante la imposición del estado y todo irá bien no nombre al consejero que usted decida porque si al estado no le gusta

ni en cataluña ni en ninguna parte ustedes saben que el ciento cincuenta y cinco se podrá levantar y aplicar a discreción que es un nuevo marco y ustedes

si no se iban a adelantar las elecciones y ustedes quieren impedir el camino a ciudadanos porque si ciudadanos hubiese querido que hubiera elecciones no hubiera votado a favor de estos presupuestos

decir que no a estos presupuestos no a la corrupción no al recorte de los derechos de los más desfavorecidos no al recorte de las libertades la alternativa era decir

sumando sus votos a un partido que sí apoya el ciento cincuenta y cinco y por el que usted me ha criticado permanentemente es coherente usted es coherente la actitud de su grupo parlamentario pues mire
isiltasuna usted critica al pnv por apoyar los presupuestos
usted dice que había otra alternativa yo le pregunto había otra alternativa presupuestaria sobre la mesa le recuerdo que la única alternativa era el no acuerdo y probablemente el no gobierno probablemente el no gobierno y esto

las personas pensionistas la recuperación las inversiones y el autogobierno el autogobierno por el que este parlamento emplazó también

para que en el plazo de seis meses pusiera sobre la mesa un plan para completar el estatuto de autonomía autogobierno con este gobierno español mire la alternativa al acuerdo era más confrontación inestabilidad tensiones

la alternativa era por supuesto artículo ciento cincuenta y cinco sine die durante más y más tiempo

la alternativa es el cuanto peor mejor cuando estoy seguro de que sí se va a levantar el ciento cincuenta y cinco erabaki honek ez dio ppren gobernuari

egun on lehendakari jauna el pasado siete de mayo

de pensionistas de euskadi le solicitaron en una rueda de prensa a usted señor urkullu

a las manifestaciones convocadas mañana sábado veintiséis de mayo a favor de unas pensiones dignas lehendakari jauna

señor martínez como lehendakari no participo en concentraciones ni movilizaciones que no sean convocadas o coparticipadas en su convocatoria por el gobierno vasco
nuestra responsabilidad es trabajar en la búsqueda de soluciones posibles eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

me apena su postura lehendakari porque eso al final demuestra que usted va a preferir marcarse un rajoy y mirar para otro lado con esta cuestión mire

ya discutimos sobre esto y usted nos llamó oportunistas pero lo que hemos visto en estas anteriores semanas

primero citaron a los colectivos pensionistas en sabin etxea para ver si les podían callar luego pactaron los presupuestos generales del estado en contra

y luego además traicionaron las demandas de miles de vascos y vascas que claman por unas pensiones dignas como lo van a hacer mañana creo que

de cómo practicar el oportunismo más salvaje ustedes han hablado y ha hablado ahora mismo también de responsabilidad al pactar unos presupuestos con rajoy casi el mismo día en el que se condena al partido popular por corruptos no son ya oposiciones informales ni periódico son sentencias

mantener en el gobierno a un partido condenado literalmente

de verdad eso es responsable pero más aún es eso bueno para euskadi de verdad es bueno para euskadi que el gobierno más corrupto de europa

a la mayoría de este país a la mayoría de euskadi al aprobar a rajoy los presupuestos de la vergüenza los presupuestos de la vergüenza por el pensionazo

por la sentencia de la gürtel por el ciento cincuenta y cinco no hay palabras

a los presupuestos de rajoy de verdad lehendakari cuando usted acaba de hablar habló ayer y se reafirmó en los buenos que eran los presupuesto para euskadi no tuvo en cuenta

que gracias a ustedes hoy tendrán peores condiciones de jubilación que uno de los colectivos más precarios con peores condiciones con mayores dificultades

una de las víctimas de sus pactos con el pp lo dice todo sobre su falta de ética por lo tanto vuelvo a preguntar por si cambia de opinión

que van a ver empeoradas sus condiciones de jubilación y les va a decir lo buenos que son

está este lehendakari a la altura de lo que le piden las pensionistas vascas

el coraje de ir a la manifestación de mañana en favor de unas pensiones dignas

de los mayores de este país tenemos un lehendakari que escucha a la ciudadanía vasca o uno que se marca un rajoy y pasa de ella esa es hoy la pregunta esa es hoy la pregunta que le hicieron decenas de miles de vascos y vascas y que esperan una respuesta y hoy usted ha preferido escurrir el bulto ha preferido vender parches como ha hecho antes antes que mirar la herida que provocan sus pactos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor martínez no sé si lo que se ha aplaudido de su bancada es la acusación de falta de ética y de falta de dignidad por la que usted

jauna mire le voy a decir lo que el gobierno vasco ha hecho y hace en relación a este tema primero trabajar para que se cumpla en todos sus términos

un acuerdo que usted promovió defendió y aprobó pero que ahora que se ha conseguido pasa a criticar y considerar insuficiente

segundo las administraciones vascas en el marco de nuestras competencias priorizamos el sistema de protección social prestando apoyo a las personas pensionistas de forma integral atención socio sanitaria complemento de vivienda ayudas de emergencia residencias transporte copago farmacéutico y lo hacemos con convicción plena el compromiso social de euskadi no tiene parangón y desde luego ustedes no lo han igualado donde han podido hacerlo

tercero el gobierno vasco a pesar de no tener la competencia

una de cada cuatro personas que recibe la renta de garantía de ingresos es pensionista destinamos cuarenta y seis millónes a este objetivo que no se conoce en ninguna otra comunidad un esfuerzo insisto

a pesar de no disponer de la competencia cuarto seguimos reclamando la gestión del régimen económico de la seguridad social esto es lo que hace el gobierno vasco me puede decir qué hacen ustedes yo se lo digo estos días mientras el gobierno vasco insiste en una explicación transparente y realista

yo no quiero ni recordarle cuál es la gran cuestión social sobre la que unidos podemos está votando y decidiendo cada cual decide su interés o dedica su interés a lo que considera prioritario

que la elección de prioridades es lo que define a cada partido eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

el artículo diez punto catorce del estatuto de autonomía del país vasco atribuye a esta comunidad autónoma la

régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de los menores penitenciarios y de reinserción social conforme a la legislación general en materia civil penal y penitenciaria

un modelo integral de intervención en materia de justicia juvenil cuyo eje vertebrador han sido los llamados planes de justicia juvenil planes que se conciben como herramientas básicas para la planificación

y que se han ido configurando como un referente de buena práctica en la respuesta que las entidades públicas deben dar a las demandas judiciales en aquellas personas menores de edad la consolidación de este modelo el desarrollo continuo de programas y servicios y la evaluación de sus resultados lo han ido convirtiendo en un modelo de referencia para muchos intervinientes y profesionales

la evaluación intermedia que se realizaba del cuarto plan de justicia juvenil que se realizaba por el instituto vasco de criminología y pudimos comprobar

en materia de justicia juvenil uno de los aspectos más relevantes que ponía de manifiesto aquella evaluación fue la reducción de la tasa de reincidencia entre los chicos y las chicas a los que les ha aplicado alguna de las medidas educativas y de rehabilitación así pudimos conocer que

de reincidencia se quedó fijada en un veintiocho punto uno en esta evaluación intermedia

inferior otro aspecto que se resaltaba era la necesaria cooperación entre los diferentes departamentos del gobierno vasco porque las acciones las lidera

con las personas jóvenes que han tenido problemas con la justicia una labor coordinada que a la vista de los frutos o de los resultados que nos daba esa evaluación intermedia podemos decir que está dando sus frutos un modelo de justicia juvenil que se basa también en la investigación constante para el tratamiento que hay que llevar sobre esas nuevas tipologías delictivas y que tuvimos también oportunidad en la comisión parlamentaria de justicia de conocer cuando nos acercamos a los centros de menores

modelo abierto del tratamiento en medio abierto porque esto nos permite un mayor éxito de los diversos programas y la implementación de las acciones en el contexto social en la propia comunidad en la que deben después de regresar estos chicos y chicas como les decía un trabajo constante que está permitiendo que este modelo de justicia juvenil que se desarrolla en la comunidad autónoma sea un referente a nivel internacional

un congreso auspiciado por la unesco que tiene por objetivo involucrar a diferentes profesionales y partes de

y prevención de delincuencia y extremismo violento y yo lo que le quiero plantear señora san josé es que desde la experiencia que se acumula en esta comunidad y desde el liderazgo que ejercen ustedes en su departamento cuáles son las aportaciones que desde su departamento van a poder realizar en este congreso mundial

un congreso mundial al que usted se ha referido en este congreso participaré junto con la directora de justicia y el responsable de justicia juvenil del departamento

participación son básicamente dos una el contenido del congreso que abordará cuestiones como la reducción de la delincuencia juvenil y la reincidencia así como la mejora de los mecanismos de protección para los niños niñas y jóvenes vulnerables incluyendo estrategias de prevención temprana y la segunda razón ampliar los contactos y las vías de colaboración internacional en esta materia el congreso mundial tiene un foro específico para los países iberoamericanos y como ha dicho en su intervención señora castelo el modelo de justicia juvenil en euskadi

área geográfica los valores y el enfoque restaurativo que aquí ponemos en práctica se ha impulsado en estos países sobre todo a raíz de la declaración iberoamericana de justicia juvenil restaurativa aprobada por la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos celebrada en la república dominicana

el foro iberoamericano está impulsado por la organización no gubernamental

y sus responsables nos han invitado a participar e intervenir en el congreso mundial de parís

aportar los resultados de nuestra experiencia de más de veinte años y extraer enseñanzas de otras realidades y establecer las premisas para futuras colaboraciones en septiembre de dos mil dieciséis se diseñó y aprobó en guatemala una hoja de ruta para la implementación de la declaración

que tienen que ver con la elaboración de documentos y normativas el fomento de la formación especializada la investigación y la gestión del conocimiento y la promoción de convenios de colaboración entre

y queremos materializar en convenios específicos intercambios institucionales para el conocimiento práctico de los modelos de intervención asesoramiento y acompañamiento de profesionales del sistema de justicia juvenil del país vasco en el diseño y puesta en marcha de nuevos modelos de intervención y trasladar nuestra amplia experiencia en elaboración de planes y en la definición y evaluación de los mismos y

otro objetivo que nos proponemos es el de articular nuestra

con enfoque restaurativo además de conseguir las relaciones oportunas para impulsar nuevos convenios queremos potenciar los convenios ya firmados sobre esta materia con chile república dominicana y con las provincias argentinas de entre ríos y santa fe junto a todas estas razones creo importante indicar nuestra presencia en este congreso mundial

dos mil catorce dos mil dieciocho y es el momento de comenzar a actualizar los indicadores de evaluación y nos será de gran ayuda tomar contacto con los modelos que se aplican en otros países de referencia como pueden ser los del norte de europa

el primero que la media de medidas impuestas está siendo de unas ochocientos cuarenta por año entre firmes y cautelares y el segundo dato que la reincidencia de los jóvenes infractores
como ya ha dicho usted se sitúa por debajo del diecisiete por ciento eskerrik asko eskerrik asko san josé

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías

o a su gobierno pero yo no me voy a deslizar tampoco por el

que hemos visto esta mañana en el pleno vamos a hablar de protección social por tanto conviene también recordar que efectivamente acabamos de llegar a un acuerdo para mejorar la situación de los pensionistas

del sistema de solidaridad en toda españa y también aquí en el país vasco

a presentar un proyecto de ley para la reforma de nuestro sistema de protección la reforma de la ley

no ha cumplido porque no ha presentado ese proyecto de ley en cambio se ha presentado la proposición de ley por parte de los grupos que

y del partido socialista de euskadi han presentado también un plan de reforma de lanbide yo considero pertinente preguntarle a usted si esa proposición que ustedes han valorado favorablemente desde el gobierno es la reforma que usted quiere hacer es la reforma que comprometió su gobierno

esa proposición por tanto puede reclamarse como también de la paternidad del gobierno y de su intención de hacer y muy importante también para nosotros dado que ustedes están en situación de minoría y que si quieren sacar adelante

si lo que contiene esa proposición es una declaración de máximos de mínimos hasta qué punto quieren ustedes cambiar

a hacer verdaderamente del empleo el centro de la política social y por tanto conseguir que nuestro sistema de ayudas no cronifiquen la percepción de esas ayudas y por tanto tenga unas tasas tan bajas como las que tiene ahora de inserción

si ustedes presentan esa proposición de ley convencidos de que hay dificultades en el control de las ayudas que se han producido casos de cobros indebidos hasta unas cantidades millónarias que se ha extendido la percepción en buena parte de la sociedad de que el sistema es discriminatorio e injusto quiero saber si usted comparte estas reflexiones que les han llevado a cambiar de posición esta legislatura y entiendo que ha comprender y aceptar
que hace falta una reforma en profundidad en los sistemas de protección para garantizar que pivote entorno al empleo eskerrik asko

sabe bien y conoce bien cuál es la dinámica y también la mecánica en relación a lo que puedan ser los deseos de presentar un proyecto de ley las circunstancias que se producen cuando

con colectivos con interlocutores políticos que reclaman también más tiempo

el agotamiento también de los plazos y en ese sentido también la mecánica para presentarlo como proposición de ley yo valoro la proposición de ley como un paso más en una trayectoria de tres décadas en las que euskadi ha demostrado

su solidaridad y apoyo a las personas que más lo necesitan y estas medidas se presentaron señor alonso hace un año en mayo del año dos mil diecisiete en este parlamento

y propuestas de cambios normativos para proteger mejor el eslabón más débil para mejorar la gestión y seguir avanzando en eficacia evitando

se han recogido propuestas de instituciones asociaciones y colectivos para mejorar el sistema vasco de protección social yo considero la reforma necesaria

para actualizar y estabilizar el sistema para adaptar la normativa a la gestión que ahora corresponde a lanbide para ajustar las medidas a las nuevas necesidades sociales

o el acceso a la formación y el empleo que es uno de los objetivos evidentemente y valoro por lo tanto positivamente las medidas planteadas las aportaciones recibidas

la contestación pero le voy a decir porque usted ha apelado en su última frase a la necesidad de consenso es difícil que esta reforma salga por consenso esta reforma tendrá que salir por mayoría si usted cree que puede implicar en una misma posición

a podemos y a pp pues eso va a ser imposible es imposible y por tanto estamos como siempre en esta legislatura en la necesidad de elegir y usted tiene que elegir

se queda corta y por tanto habrá que apretar si se quiere llegar o alcanzar un acuerdo con la posición de mi grupo

la pasada legislatura que nuestras proposiciones no fueran nunca tenidas

y que se negaron todos los argumentos que ahora ustedes están utilizando para justificar la reforma por tanto tenemos muy poco incentivo señor lehendakari y es muy difícil que

seguramente es diametralmente opuesta entre lo que piensa el partido popular y lo que piensan los señores de bildu o los señores de podemos de manera que yo le digo con claridad si quiere apoyo elija usted elija con claridad

esta legislatura hemos adoptado medidas de revisión del procedimiento interno de trabajo

para mejorar la gestión y el control del fraude hemos ampliado la coordinación con la seguridad social hemos puesto en marcha un protocolo con las policías locales estamos implementando el sistema de identificación de la huella basado en parámetros biométricos hemos mejorado las iniciativas de integración laboral

no partimos de cero señor alonso desde hace treinta años euskadi invierte en garantizar la cohesión y la inclusión social las medidas de mejora han sido continuas y ahora se plantea una nueva reforma con la profundidad en el diagnóstico con la concreción en las medidas el tiempo y las aportaciones que esta cuestión merece

necesitamos extender el apoyo necesitamos extender el consenso y la propuesta está abierta al apoyo de los grupos incluido el suyo señor alonso para lograr los objetivos

preservar el modelo mejorar su gestión y priorizar la integración laboral de las personas que se encuentran en la necesidad de recibir esta ayuda beraz

cumple su programa y vamos a mantener la prioridad social y garantizar todas las prestaciones con rigor y seriedad este es nuestro compromiso

la estatalización de las relaciones laborales en nuestra comunidad es un fenómeno creciente y que recibe un impulso político con diferentes alianzas

en siete años el número de trabajadores vascos y vascas que han pasado a tener o a estar bajo la dependencia de un convenio de ámbito estatal ha pasado del veintiuno por ciento al treinta y cuatro por ciento en siete años entre los convenios firmados o renovados en el año

han visto un convenio renovado en un ámbito estatal y solo

autónoma vasca esta estatalización de las relaciones laborales se impulsa a través de la centralización de la negociación colectiva y la promoción de acuerdos de ámbito estatal que en algunos casos llegan incluso a prohibir que se firmen acuerdos en entidades territoriales de ámbito menor en el caso

provinciales una centralización premeditada en la cual se aúnan los intereses de ciertos sindicatos que son más fuertes que aquí con la de las patronales tanto la de aquí como la de allí que saben que en ese ámbito pueden imponer peores condiciones laborales y salariales se da el bloqueo además de los convenios

y el bloqueo lleva a través de las medidas implementadas por las diferentes reformas laborales

de ámbito estatal tampoco accede la patronal vasca a abrir nuevos ámbitos de negociación en aquellos espacios

regulados por convenios de ámbito estatal y por tanto no se puede

el rango de los convenios negociados en el ámbito vasco y finalmente desde el sector público se están impulsando medidas que centralizan y que imponen desde madrid las relaciones en el ámbito del empleo público en cuestiones como salarios tasas de reposición o incluso como hemos visto

se firmó entre otras medidas un acuerdo de estructura que pretendía dar

a los convenios de ámbito vasco un acuerdo que no ha funcionado porque no se ha llenado de contenido ya que la patronal no ha accedido a levantar el pie del acelerador

la actual legislación laboral hecha a medida para dejar de caer los convenios para poder imponer unilateralmente

este acuerdo de estructura además de no llenarse de contenido se ha visto amenazado con su desaparición mediante la impugnación que hizo una patronal impugnación ante la cual cierto que una parte de su gobierno se posicionó públicamente en contra y pudimos escuchar a la consejera del ramo

yo por lo menos no le he oído y me hubiera parecido importante que lo hiciera

de las relaciones laborales es importante decidir aquí también sobre estas cuestiones por democracia por respeto al autogobierno

por poder tomar las decisiones cerca del ámbito en el que van a ser aplicadas es importante y también es importante para mejorar las condiciones laborales y salariales

y eso es algo que hablando con los trabajadores y trabajadoras podemos constatar

incluso los sindicatos o los afiliados o los simpatizantes de sindicatos de ámbito estatal entienden que siempre es mejor negociar en el ámbito vasco porque se pueden generar

social política y económica entre otras cosas a un mayor nivel de vida y mejores oportunidades salariales los trabajadores y trabajadoras vascos llevan apostando hace tiempo de forma creciente por un sindicalismo propio y ya es

absolutamente mayoritario el sindicalismo de ámbito vasco una realidad que va creciendo usted se posicionó también señor lehendakari en el pleno de política general a favor

con el trabajo y la regulación de las relaciones laborales entren dentro del ámbito del autogobierno y también su partido en el ámbito del debate

y el nuevo estatuto ha subrayado la importancia de que las relaciones laborales

del espacio de autogobierno por esas cuestiones que hablaba de una mayor democracia por la existencia de un sistema propio de agentes sociales y de unas peculiaridades propias de nuestro sistema económico productivo y político qué está usted haciendo y qué va usted
a hacer para que eso sea una realidad eskerrik asko casanova jauna lehendakari jauna zurea da hitza

de que lo que haya podido decir la consejera de trabajo y justicia está planteado incluso en consejo de gobierno y ratificado por el propio consejo de gobierno y por mí por lo tanto también como lehendakari

corresponde a estos dos actores el gobierno incentiva facilita impulsa instrumentos que favorezcan la concertación y la negociación

y reseñar en este pleno de hoy con el consejo de relaciones laborales con el consejo general de osalan el consejo económico y social el comité de elecciones sindicales el consejo de administración de lanbide consejo vasco de formación profesional consejo de familia consejo de servicios sociales patronato de hobetuz

favorecemos el encuentro entre quienes quieren encontrarse y participar y aportar por lo tanto quiero recordarle que solo en la administración general de nuestra comunidad contamos órganos colegiados treinta y dos órganos colegiados que están activos y en los que participan los sindicatos esa mención por lo tanto al diálogo social existe el diálogo entre quienes quieren y foros existen para que se

confebask y los cuatro sindicatos vascos alcanzaron un acuerdo unánime para dar preferencia a los convenios vascos sobre los de ámbito estatal fueron confebask y los cuatro sindicatos vascos y este acuerdo tiene vigencia indefinida y es de aplicación

la negociación colectiva y hacer prevalecer los convenios vascos sobre los estatales en todo caso el objetivo del gobierno es lograr más

el informe económico del bbva proyectaba una reducción de las tasas de paro en euskadi tasas que en función del escenario de estabilidad y la mejora continua de la economía podrían bajar del diez por ciento este año y del nueve por ciento el que viene y es una buena noticia nuestro objetivo

remar juntos todos los agentes remar juntos para seguir incrementando la productividad y la mejora de los salarios en definitiva mejorar la competitividad de nuestras empresas

no es la primera vez que usted presenta interpelaciones al gobierno y mociones en esta cámara tampoco

con su voto un acuerdo que aboga por derogar la reforma laboral un empleo estable y de calidad impulsar la negociación colectiva sobre la base del acuerdo del diecisiete de enero

y la necesidad de acometer una subida de salarios en el marco de la negociación colectiva insisto en el marco de la negociación colectiva y atendiendo a la realidad de cada empresa

coincido señor casanova y así me manifiesto precisamente rebajar la tasa de paro mejorar la calidad del empleo y contar con profesionales adecuados son los tres retos que señala también el informe del bbva

y reitero también que la evolución de los salarios corresponde a la negociación colectiva esa que es responsabilidad de las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales y me consta que las empresas vascas ya están acometiendo la adecuación de los salarios así lo dije también

a pesar de recibir también críticas por la demanda de incremento salarial también en relación a lo que fueran las realidades de cada empresa

será una noticia positiva porque incide favorablemente en el consumo y es señal inequívoca de que se consolida la recuperación

que se dirija a la patronal con la misma agresividad con la que se dirige a algunos sindicatos a la mayoría prácticamente

sí con la asertividad que usted sea capaz de mojarse y de arrancar compromisos más concretos definir etéreamente que hay que subir los salarios y luego cuando no le hacen caso aceptar esa negativa

es importante cuando en esta misma cámara por parte por ejemplo del señor alonso se le ha planteado que cuidado con mayores exigencias entorno al derecho a decidir porque puede perder el derecho a decidir que tiene actualmente cuando ayer mismo por parte del representante del partido popular

se le dijo que ellos son garantía de que eso que se está hablando y acordando en la ponencia de autogobierno no se va a llevar a cabo cuando ustedes retrasaron la negociación o la aprobación de los presupuestos no tanto por lo que estaba pasando en cataluña

alguna transferencia que hasta última hora lo intentaron y no lo consiguieron porque el gobierno tiene absolutamente claro

ninguna transferencia no ya nueva sino de las que están pendientes y aceptadas y son de obligado cumplimiento cuando entendemos que el estado y el partido popular con el que ustedes

comparten política sobre el modelo de estado y también política económica no está dispuesto

de lo que ya está comprometido pues usted tendrá que plantear algún tipo de estrategia para avanzar y yo no le veo en ese terreno

porque si decíamos que la estatalización la estatalización ha permitido que se den condiciones para deteriorar las relaciones laborales tiene que haber una segunda parte y es una patronal

que está aplicando esa reforma para beneficiar a sus intereses y es una patronal además que se está beneficiando

política y social son las gafas de confebask y desde esas gafas

cuando aquí décimos que hay crecimiento económico del producto interior bruto todos lo aceptamos porque es un dato objetivo pero cuando décimos que los salarios no están subiendo que los trabajadores pobres se están multiplicando que las pensiones

cada vez son menores entre otras cosas por la contra reforma fiscal que ustedes al dictado de confebask han implementado

esa supuesta recuperación una mayoría de este país y a esa mayoría no está llegando

las gafas de esa mayoría social están una y otra vez compartiendo mesa y mantel

como un verdadero órgano de expresión de este gobierno como pasó la vez pasada la semana pasada en la reunión de cebek

ciudadanía y su actitud cómplice es la que está permitiendo que se esté dando este deterioro en las relaciones laborales y en el mercado laboral por tanto le pedimos primero y segundo responda si en el ámbito del autogobierno ustedes tienen previsto hacer algo concreto además de palabras para que se respete la voluntad

también en el ámbito de la construcción de un marco vasco para las relaciones laborales eskerrik asko casanova jauna lehendakari jauna zurea da hitza

recurrentes a pesar de que la verdad sea otra mire yo esto alineado

una política de colaboración una política de acuerdo una política de consenso y no estoy alineado con lo que es una política de confrontación ni de enfrentamiento

no con las estrategias de agentes que puedan estar más interesados en lo que pueda ser el desencuentro que provoque destrucción de empleo y destrucción de empleo con calidad

osoari ere mire señor casanova yo le invito a que lea usted

y lea también las declaraciones de algunos empresarios con respecto a lo que yo dije

en los medios de comunicación sí léalo léalo le invito a que lo lea pero de principio a fin y aplique un principio de realidad el director general de la organización internacional del trabajo en la conferencia sobre el futuro del trabajo que queremos con motivo del centenario de la oit

y le cito textualmente el trabajo está en una encrucijada por un lado persisten los efectos de crisis recientes que han dejado un rastro de desempleo

el impacto de las nuevas tecnologías sigue el envejecimiento de la población los flujos migratorios los efectos del cambio climático los cambios en las relaciones del trabajo

son algunos de los factores de cambio que alimentan las discusiones sobre el futuro del trabajo y se preguntaba también de dónde saldrán los empleos del futuro cómo serán esos empleos viviremos mejor ba begira casanova jauna

el camino señor casanova para afrontar las relaciones laborales en el nuevo escenario de cambio global es la cooperación y no la confrontación creo que en un nuevo modelo de empresa más inclusivo y participativo

una proposición no de ley para la promoción de un nuevo modelo de empresa el camino para dar respuesta a los retos que plantea la propia organización internacional del trabajo

pasa por la colaboración y no la confrontación pasa por un nuevo modelo de empresa más abierto a la participación y más inclusivo

a que actualice sus propuestas y tenga en cuenta los factores de cambio en orden a avanzar en los nuevos modelos que recomienda la oit y que tienen como referencia realidades muy cercanas a nosotros eskerrik asko

gaur trebiñu mahai gainean gaur arabako zortzigarren eskualdea legebiltzarrean en el año mil novecientos noventa y cinco

una ponencia del senado ya instaba a avanzar en el tema territorial garantizando servicios a la población hoy no tenemos solucionado ni el tema territorial de treviño en araba ni siquiera servicios básicos servicios básicos que corresponden también

veinticinco años donde los intereses partidistas han neutralizado los derechos de las personas que viven en treviño veinticinco años donde se han perdido derechos se han perdido oportunidades y lo peor de todo no se ha escuchado la voluntad de las personas que viven allá

en el año noventa y cinco y se han seguido haciendo se han cumplido

o ha quedado en una mera frase hecha y ya prácticamente olvidada porque este gobierno realmente no lo puede decir porque este gobierno se lo cree desde euskal herria bildu décimos alto y claro trebiñu araba da

y la respuesta es bien sencilla no hay ni intereses económicos ni hay beneficios ni muchos votos

de hecho este tema prácticamente no interesa económicamente treviño además

que no está dispuesto a aceptar ningún palo en la rueda en estas negociaciones económicas que no políticas que lleva a cabo en madrid baina esan beharra dago

beste hogeita bost urte desde hace veinticinco años ha pasado ya una generación ha pasado una generación donde el gobierno vasco ha jugado a pequeña

en el tema territorial una generación de personas a quienes se les ha impedido opinar

una generación que ha perdido ya el derecho a ser vasca el derecho a ser alavesa y que muy a su pesar sigue teniendo que rendir cuentas en burgos y en valladolid el pnv está haciendo política de espaldas a las personas hoy

y les voy a dar un ejemplo que demuestra esto justo hace una semana en el pleno

se leía una declaración institucional donde se pedían claramente dos cosas dos cosas muy sencillas

para seguir los convenios firmados sin limitaciones de competencias

saben lo que votó el partido que hoy sustenta al gobierno votó que no

de esta declaración institucional uno euskal herria bildu ciudadanos del condado asociación independiente y ciudadanos por treviño y en contra

un voto de la alcaldesa que votó en contra incluso de su propio partido dos votos del partido popular y un voto del pnv así que concretamente se negaron a reunir urgentemente la comisión de seguimiento para lograr un convenio global fijar una ruta

claramente el pnv se mostró unido al pp y en contra de esto quisiéramos una razón por la que no interesa fijar una hoja de ruta díganos una sola razón

hay algún interés que nos estamos perdiendo ahora mismo ustedes están negociando para ciertos intereses económicos creo que lo he dicho no políticos y estas negociaciones duelen

en estas negociaciones que aun difíciles de asimilar es verdad que son fáciles de entender después de esta semana histórica de vaivenes políticos de vaivenes económicos un sentimiento de traición es lo que treviñeses y treviñesas

un sentimiento incluso de abandono veinticinco años después tienen ustedes la casa sin barrer los deberes sin hacer les están fallando y sabemos que un cambio de dirección y una apuesta valiente y arriesgada puede suponer perder votos es verdad

son valores que una vez perdidos pues no se recuperan eta beste kontu batekin joango naiz datorren ekainaren hamazazpian argantzunen

vamos a ir a treviño vamos a hacer los deberes apustua argi eta garbi izan beharko da

entre todas las administraciones vascas burgalesas incluso del estado español pero hoy aquí ustedes no están cumpliendo con las suyas con su parte exclusivamente señor urkullu mi pregunta es absolutamente fácil y mi interpelación es muy sencilla de responder

para hacer de una vez por todas caso en incluir treviño en araba urkullu jauna esadazu benetako pausuak emango dituzula

bai kaixo berriro eta eskerrik asko esta semana es la semana del fraude señor erkoreka me acaba de defraudar la pregunta era absolutamente concreta qué pasos va a dar de aquí a futuro yo no he dicho lo que no se ha hecho

es que estamos hablando de territorialidad y de derechos entonces esto es un fraude absolutamente porque no me ha respondido qué piensan hacer adelante de momento nada cuántas generaciones van a tener que pasar otra vez para que treviño esté en álava pero no lo digo yo

actual porque es de la semana pasada en la que usted me habla de los famosos convenios ya famosos y

y estamos hablando de falta de resolver asuntos en relación con la recaudación la vialidad invernal agencias de desarrollo agricultura sanidad educación transporte capítulo aparte pone literalmente estoy leyendo el hecho de que falte por tratar y resolver el tema territorial a pesar del mandato de la ponencia del año noventa y cinco no lo digo yo yo soy nueva en esta cámara no sé si para bien o para mal hay otros que no son tan nuevos tampoco sé si para bien o para mal lo que solicitan aquí es que se reúna urgentemente la comisión de seguimiento para

de ruta para culminar la libre decisión democrática de los treviñeses y su partido votó en contra es que es algo tan sencillo como eso

o sea de mapas y de geografía y de historia sé bastante eso ya lo sé

treviño o sea que me separe el tema territorial con el tema de los derechos básicos o sea por favor los treviñeses estudian en euskera los treviñeses estudian en gasteiz

hagamos nuestras competencias no echemos balones fuera hoy yo creo que toda la mañana llevamos haciendo una especie de ventilador y poniendo responsabilidades en el resto me gustaría que asuman y que miren para adelante efectivamente para atrás

en los que ni las propias personas que viven en treviño o sea los asumen ni los aceptan y dicen que son absolutamente insuficientes nome lo estoy inventando yo lo pone aquí entonces sin más yo pedirle por favor sí efectivamente vamos a presentar una moción volvemos a traer el tema de treviño igual es porque soy nueva vale pues volvemos a traer el tema de treviño a esta cámara

entendiendo que tiene que ser un trabajo coordinado entiendo que encima tenemos que

pero nosotros vamos a estar disponibles claro que hay que mirar para atrás pero hay veces que conviene mirar para adelante y hoy es un día de esos y esta semana es una semana de esas eskerrik asko

señora lópez de arroyabe yo también soy nuevo en esta cámara soy nuevo en esta cámara así que yo

ahora ya no soy parlamentario pero nunca antes he estado como parlamentario ocupando escaño como usted en esta cámara jamás antes de ahora en otros foros parlamentarios sí pero en esta no lo que pasa es que claro

de manera cabal de manera equilibrada documentándome bien me dice usted ha hecho historia no no yo no he hecho historia yo he procurado hacer lo que usted no ha hecho para aportar aquí una información equilibrada para no transmitir a la cámara una visión en virtud de la cual

es el acuerdo del senado del año de mil novecientos noventa y cinco y todo lo demás ha sido fraude todo lo demás ha sido incumplimiento todo lo demás ha sido desasistencia perdone no ha sido así aquí hay una historia de iniciativas de actuaciones algunas bien otras mejor planteadas otras con deficiencias sin duda con dificultades jurídicas serias que usted no se le ocultan

para evitar su fraude si esta es la semana del fraude efectivamente usted quería hacer un planteamiento fraudulento a la cámara y hacer desde el planteamiento

a partir de ahí yo conozco la iniciativa a la que usted se refiere

estamos hablando de una declaración institucional aprobado por de los dos ayuntamientos constituidos en el enclave uno de los dos no el otro solo uno

una declaración institucional se acuerda por unanimidad en esta cámara o hay unanimidad o no hay declaración institucional que yo sepa y suele ser así en todas las cámaras y en todos los foros representativos bueno pues en este ayuntamiento es declaración institucional pero

sino por una mayoría de cinco contra cuatro cinco contra cuatro el otro ayuntamiento del enclave no ha adoptado ninguna decisión a este respecto desde luego no ha hablado este planteamiento

hasta que punto hace un planteamiento que se puede o no compartir pero que tiene su aquel mire primero es una declaración institucional le decía

dice que sin limitaciones de competencias sin limitaciones de competencias fíjate yo no sé

este parlamento tampoco el gobierno vasco tampoco dice que sin limitaciones de competencias se pueda negociar y lograr no ya negociar lograr un convenio global definitivo que satisfaga las necesidades que realmente demandan los habitantes del condado

hay dos cosas aquí un convenio global definitivo y segundo una hoja de ruta que culmine la decisión libre y democrática de los treviñeses los dos asuntos que yo le apuntaba que seguramente no convenía mezclar

porque al final el riesgo que se corre es que no se alcance los objetivos ni de la una

ni del otro es el riesgo que se corre en este planteamiento yo le puedo asegurar una cosa aquí a lo que se insta es a constituirse la comisión de seguimiento la comisión de seguimiento creada por los acuerdos suscritos recientemente en las diputaciones

una comisión de seguimiento que por propia definición como todas las comisiones de seguimiento están integradas por representantes de las dos instituciones que suscriben el convenio

vamos a romperle las costuras a esa comisión de seguimiento

de manera que en lugar de estar integrada esa comisión de seguimiento por representantes de las dos instituciones

vamos a incorporar a la junta de castilla león al gobierno vasco a otras instituciones a los propios ayuntamientos para que sin limitación de competencias decida todo lo que afecta a treviño al gobierno vasco hasta la fecha nadie le ha invitado a formar parte de ni de este ni de ningún otro foro de la misma naturaleza

si se invita si se le invita al gobierno vasco ya decidirá pero claro con perspectiva con viabilidad con razonabilidad sin demagogias de manera que se puedan plantear los asuntos con racionalidad

usted hacer aquí que se crean los foros que sean no la comisión de seguimiento porque la comisión de seguimiento por definición no puede integrar a otras instituciones distintas de las que han firmado el convenio esto es romperle las costuras al órgano y darle una orientación y una prohibición completamente distinta

vamos a ser serios por favor en este tema vamos a dejar de hacer fraude en la semana del fraude por favor

lantegi bat horrela gaur egun egoten da no hemos venido a hablar de patrimonio arquitectónico porque esto podría ser otro debate

de unos terrenos que desde nuestro punto de vista son estratégicos unos terrenos muy bien ubicados unos terrenos

con unas excelentes comunicaciones y unos terrenos que podrían ser

en la margen izquierda le pedimos a usted no ya desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial pero sí desde el punto de vista que es la máxima rectora de la política

si entra dentro de su agenda que estos terrenos se rehabiliten y se oferten en su integridad como terreno

gaztelaniaz irakurriko dizut el fomento de la situaciones necesarias y adecuadas que alienten

lo que hizo el consejo de administración dado que existían intereses para poner en marcha

acordar la enajenación de esos terrenos han sido enajenados a una empresa que se denomina

que es quien va a desarrollar esos terrenos industriales por tanto la actuación desde el punto de vista de suelo

hemos conseguido que un promotor privado ponga además a disposición de

dentro de la ordenación correspondiente y a partir de ahora nos toca trabajar con otras herramientas para una vez gestionado el suelo

industriales y no es menos cierto y usted lo conoce que este mismo martes se ha aprobado en consejo de gobierno el nuevo programa indartu

ampliada que también servirá para traer nuevas inversiones a ese terreno eskerrik asko eskerrik asko

son absolutamente impresionantes quizás usted desde ahí no lo vea pero estoy seguro que en más de una ocasión ha tenido oportunidad de verlo más de cerca estamos hablando de esta zona que es la que he enseñado las fotografías esta zona es el polígo no ibar zaharra y está aquí también esta otra zona

pende una proposición para su recalificación y su uso para actividades terciarias en concreto para posibilitar la instalación de la empresa amazon

a clasificar y ordenar cajas y repartir cajas no a una actividad por eso le preguntaba a ver si querían dedicar actividad industrial el conjunto de los terrenos es una superficie

la asociación de patrimonio dice que ocupa lo mismo que

y es una superficie que se le puede y se le debe dar utilidad ustedes por ejemplo quieren llevar un parque tecnológico

sin urbanizar y sin artificializar en una comarca ayer mismo lo recordábamos en la ponencia que si sufre como una de sus carencias la falta de espacios libres y la falta de espacios naturales y ustedes quieren artificializar

mantienen en el abandono a zonas que perfectamente podrían cumplir esa función mire

ha sufrido un proceso de tercialización que está detrás de las malas situación socioeconómica que vivimos ayer mismo presentamos las conclusiones de la ponencia que ha estudiado en la realidad ezkerraldea necesita salir adelante

y para eso necesita que los suelos industriales que puedan albergar esas actividades se pongan en valor se rehabiliten

que ocupen ese suelo recalificar y tercializar va en la dirección contraria si a ezkerraldea algo le sobra son supermercados y además alguno que venga

empleos esta empresa amazon en concreto es famosa en el mundo entero por la precarización de sus condiciones laborales por su conflictividad laboral y además como usted perfectamente sabe está abocada a un proceso de automatización de los procesos de reparto y de gestión de la paquetería que
acabarían a corto plazo también con los pocos puestos de trabajo que se crean eskerrik asko casanova jauna tapia anderea zurea da hitza

parte de esos suelos han sido disponibles y se han utilizado

y hace referencia a uno precisamente en el que no podemos actuar el tema de la recalificación también sabe usted precisamente

que no depende de la actuación del gobierno ahora bien también le voy a hablar

y hablamos de actividades logísticas como si no fueran importantes

de una empresa como mercadona con un almacén automático con una serie de actuaciones de primerísimo nivel vamos a despreciar ese tipo de actuaciones

igual que una empresa que se dedica a hacer software es industria pura manufacturera no

sí por tanto son actividades que realmente no es lo mismo mover un paquete

pero hay en muchas ocasiones que existe ese valor añadido que llega de una forma se realiza un proceso y sale de otra forma

superficial sino de una forma profunda y analizando cada cosa en su lugar en cualquier caso el cómo se recalifican los terrenos depende como usted sabe absolutamente

artolazabal anderea permítame empezar

tuviera que irse del pleno el jueves pasado mientras estábamos hablando de la precariedad de la juventud que es competencia de su departamento pero hoy no veamos a hablar de eso aquí espero que habrá tomado nota pero

pleno un tema ligado directamente también con la calidad del empleo es decir queremos hablar de la calidad de la formación profesional para el empleo y lo que es más importante aún si cabe de la situación o de la no situación de las personas que trabajan como formadoras profesionales

a continuación saldrá usted y nos dirá que es importante la calidad en la formación como condición para la calidad en el empleo y que cómo no eso no es posible sin buenas profesionales formadoras lo sabemos y lo compartimos pero traemos hoy este tema

dos importantes iniciativas parlamentarias que directamente influyen en las personas en general y en el personal docente en particular nos estamos refiriendo como usted sabrá

de formación profesional del país vasco que lidera el departamento de educación y por otro lado a la reforma de lanbide servicio vasco de empleo que usted señora artolazabal lidera

sería desde nuestro punto de vista imperdonable que nos olvidáramos de las personas en este caso de las personas formadoras en elkarrekin podemos creemos que estos dos temas formación profesional y empleo deberían debatirse de manera conjunta o al menos deberían estar perfectamente coordinados para poder así marcar una estrategia global y común porque conviene recordar que cuando hablamos de formación profesional o de formación profesional para el empleo

estamos hablando de establecer estrategias que permitan el desarrollo de euskadi hacia una sociedad del conocimiento y hablamos también de la consecución de un crecimiento realmente inclusivo y sostenible y eso pasa sin duda alguna por cuidar a las personas a las personas que necesitan y que reciben

pero también y sobre todo a las profesionales de la formación para el empleo personas profesionales que deben ser reconocidas y respetadas tanto en la futura ley de fp como en la reforma de lanbide porque ese reconocimiento

no se está dando en la actualidad y esto no es un titular de elkarrekin podemos como usted ha dicho alguna vez ni espero que se sienta dolida como también alguna otra vez

han dejado claro que no debe vaciarse de contenido las labores de técnicos y orientadores ni debe primarse la externalización

contratadas por la dirección de lanbide porque señora artolazabal tenga usted claro que esta no es la manera de asegurar la calidad de la formación para el empleo ni es la forma de garantizar el derecho al empleo de la ciudadanía vasca y mire y me duele tener que decir esto

este colectivo de formadores y formadoras para el empleo directamente no existe o que ustedes como gobierno vasco y de forma deliberada han decidido que tales profesionales y trabajadoras no existan da la sensación que esta administración no cree conveniente

ni en la ley de fp ni en la reforma de lanbide se recoge ninguna idea que de alguna manera muestre la más mínima intención de este gobierno

ninguna y en este punto creo que es importante recordar que la formación es un derecho y uno de los servicios que oferta el propio lanbide para mejorar las posibilidades de la ciudadanía vasca a la hora de conseguir

y cuando hablamos de ciudadanía vasca hablamos de toda la ciudadanía vasca hablamos de personas desempleadas de trabajadores y trabajadoras en activo de autónomos

y por desgracia señora artolazabal la formación profesional para el empleo tiene una imagen tiene la imagen de que es una formación de bajo nivel y de escasos resultados que se dirige a las personas con baja cualificación o desempleadas pero la realidad nos demuestra

desde dirección hasta almacén una formación para todo repito todo tipo de empleo pero lo más grave es que esta percepción ha derivado en que la formación para el empleo se haya convertido en un lucrativo negocio especialmente para empresas cuya finalidad no es ni la

con un sector que se ha desregularizado cada vez más además

mire por ejemplo por poner un ejemplo actualmente señora artolazabal nos encontramos en una realidad en que vemos autoescuelas dando formación de castellano mientras encontramos las aulas de las epa vacías

página web de lanbide que se pone a disposición de la ciudadanía vasca un servicio de acompañamiento y orientación

y aunque no se recoja entiendo o al menos me gustaría entender que esta búsqueda se refiere a empleo digno y de calidad pues bien para ello y aunque pueda sonar trivial y parezca de sentido común

debe ser el primero en dar ejemplo lanbide debe ser el primero en dar ejemplo señora artolazabal lanbide debe asegurar que la situación laboral y profesional

ya que resultaría un tanto extraño por decirlo de alguna manera que desde lanbide servicio vasco de empleo no se respetaran los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras y es que además de extraño sería ridículo y una incoherencia por su parte señora artolazabal pues bien ustedes en ningún momento hablan del modelo de calidad que debe ofertarse en la formación para el empleo

inevitablemente por el reconocimiento de estos profesionales y de estas profesionales y por el ineludible apoyo que el propio servicio público

la realidad evidencia que el perfil profesional de los y las formadoras para el empleo

por este gobierno no está reconocido señora artolazabal nos encontramos con un cuerpo docente de formadores y de formadoras para el empleo que no está ni acreditado ni estructurado ni reconocido profesionalmente

para acabar señora artolazabal le voy a hacer dos preguntas muy simples

y no tengamos que dejarla como en tantas otras ocasiones para mandarlas por escrito simples cree usted señora artolazabal

es necesario que haya también calidad en la formación y la segunda cree usted señora artolazabal que es necesario contar con un cuerpo de docentes

cualificado reconocido y con derechos eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

este gobierno señor bollain es consciente de la importancia que el personal formador tiene relación con la calidad de la formación impartida y por tanto

personas usuarias de la misma lanbide dispone de un fichero de personal formador en el que se registra el personal docente autorizado para impartir especialidades formativas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ya sean conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad o no y en dicho fichero está claramente estructurada la formación que las personas

puedan impartir especialidades formativas completas o módulos que componen el itinerario formativo de las mismas si este es modular o modalidad de impartición presencial

en el caso de los certificados de profesionalidad los reales decretos reguladores de los mismos detallan las prescripciones que el personal formador debe acreditar para poder

por el que se regulan los certificados de profesionalidad se recoge que los centros que imparten la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad

es lanbide en la web del organismo como usted dice pueden ustedes acceder al catálogo de centros colaboradores en la formación los cursos subvencionados por lanbide se imparten en centros colaboradores públicos y privados tales como institutos de formación profesional centros de estudios y academias

en el citado real decreto también se recoge que para que los centros puedan impartir cada uno de los módulos formativos las personas formadoras deberán reunir los requisitos específicos que se incluyan en cada uno de estos módulos y su cumplimiento se verificará mediante acreditación

estos requisitos deben garantizar el dominio de los conocimientos

así se verifica mediante acreditación o experiencia profesional en el campo que la persona formadora tiene las competencias necesarias para actuar como docente en el módulo formativo

requerida la persona docente o experta debe estar en posesión del certificado de profesionalidad de formadora ocupacional o el de certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo adicionalmente además aquellas personas tutoras formadoras que imparten formación mediante teleformación deben cumplir con lo expuesto hasta ahora aparte de cumplir con los expuesto hasta ahora deben acreditar una formación

y en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en aquellas especialidades formativas no conducentes a la obtención de los certificados de profesionalidad dichas prestaciones están establecidas en los correspondientes programas formativos de las mismas

para impartir una determinada especialidad el personal técnico de lanbide encargado de la gestión y supervisión de cada acción formativa

por una entidad de formación como docente cumple los requisitos establecidos para poder impartirla y me sorprende el comentario que ha hecho diciendo que en las autoescuelas se da castellano

lo que es el control que desde lanbide se realiza tiene que certificar que el curso de formación el profesional que imparte esa formación esté adecuado realmente con

hago también una referencia a la calidad del sistema de formación profesional para el empleo y esta calidad se garantiza por medio de dos

uno el registro de entidades de formación y salvo que las empresas que realicen la formación con medios propios el hecho de estar inscrito previamente a la publicación de las convocatorias en el registro es un requisito de obligado cumplimiento para cualquier entidad de formación por tanto tienen que estar registradas en este registro

reúnan una serie de requisitos en cuanto a instalaciones equipamientos y recursos humanos marcados en las especificaciones técnicas del catálogo de especialidades formativas

y también vista de comprobación presencial de instalaciones equipamiento y parte de los recursos humanos destinados a la gestión del centro

yo no lo creo creo sinceramente que los profesionales de lanbide

miran si los equipamientos están adecuadamente habilitados y que las condiciones que los recursos humanos destinados a la gestión del centro

y este registro además se complementa con el catálogo de especialidades formativas una especialidad formativa como sabe usted es la agrupación de contenidos de competencias profesionales

técnicas que son aquellas condiciones para la impartición de la formación a nivel de infraestructuras equipamientos y recursos humanos pueden ser de dos tipos de certificados de profesionalidad reguladas por el real decreto o también inscritas

sea homogénea garantizando unos estándares de calidad que permitan que las personas que cursan la formación en lanbide tengan derecho a la obtención de un título o en el caso de la formación asociada

además determina las horas de formación que ha de tener una acción formativa

las comprobaciones realizadas por lanbide de cara a dar de alta una especialidad formativa o reformar las existentes

y son necesarias por tanto para la cualificación de los trabajadores por tanto lanbide realiza esas comprobaciones y en cuanto al fichero de docentes

profesional para el empleo ha de contar o tener en plantilla docentes que reúnan la titulación o experiencia profesional exigida en las especificaciones técnicas

las personas técnicas de lanbide comprueban mediante documentación probatoria la vida laboral o titulaciones académicas de todos los docentes también existe un registro de la competencia que incluye el de los certificados de profesionalidad y lanbide registra los resultados de la formación realizada por todos los participantes en las acciones formativas

la correcta realización de orientación en itinerarios formativos y la racionalización

y de esta forma se realiza un correcto seguimiento de las trayectorias formativas y el segundo instrumento para la calidad del sistema de formación profesional para el empleo

el diagnóstico de las necesidades formativas se realiza mediante una metodología de análisis

el análisis de los planes estratégicos y estrategias como la europea dos mil veinte

el diagnóstico de necesidades formativas fue publicado en dos mil dieciséis dentro de la propia convocatoria y en dos mil diecisiete como ámbito de mejora también se han incluido

y permitir que todos ellos tuviesen la oportunidad de acreditarse o inscribirse en aquellas especialidades formativas este proceso es riguroso

formativas financiadas en las distintas convocatorias financiadas por la administración pública

el personal técnico de lanbide lleva a cabo un seguimiento y evaluación de las acciones formativas a través de visitas a las entidades durante el desarrollo

de intercambiar opiniones tanto con el personal formador como con el alumno durante dichas visitas se aplican encuestas de evaluación y de seguimiento y por tanto para que tengamos calidad en el empleo tenemos que tener calidad en la formación

está permanentemente trabajando

estamos cumpliendo estrictamente lo que se recoge en la normativa relacionada con la formación para el empleo y asegurar de esta forma la calidad tanto de la formación
como de las personas que lo imparten eskerrik asko

señora artolazabal una vez más no me ha respondido no me ha respondido

y verifique usted lo de las clases de castellano en autoescuelas ya que es

a una solicitud de información por parte de elkarrekin podemos pero mire señora artolazabal en la plantilla de lanbide sí existen como usted dice diferentes categorías donde se engloban a las personas formadoras

dónde están los derechos y el reconocimiento de las personas porque por vergonzoso que parezca no existe reconocimiento profesional de formadoras para el empleo no existen ni acreditaciones ni ficheros de expertos por familias no se generan bolsas de empleo o listas

el empleo de las personas formadoras es sumamente precario no existe regulación salarial no existe ningún tipo de vinculación con los profesionales por parte de lanbide y únicamente

las horas de experiencia la certificación docente y las evaluaciones satisfactorias tres aspectos señora artolazabal todo el peso de la calidad de la formación recae sobre los y las formadoras formadoras que además carecen de ningún tipo de apoyo fíjese

que se hagan cargo de todas las funciones propias de la docencia pero con contratos únicamente por impartición y sí señora artolazabal el certificado profesional

tiene un programa elaborado y es oficial pero sin embargo no existen materiales de base homologados qué quiere decir esto señora artolazabal pues que cada centro o docente utiliza lo que tiene puede o está dispuesto a pagar con el presupuesto para materiales

los centros tienen impunidad para decidir las condiciones de los docentes y no existe ninguna entidad que regule esto y todo esto señora artolazabal revierte en la calidad y revierte en la capacidad o más bien en la incapacidad de las personas a acceder a una formación de calidad y esto no es algo que nos inventemos nosotros en una respuesta por escrito que usted misma nos facilitó el pasado trece de marzo dice literalmente

en la impartición de una acción formativa depende de la relación contractual entre la empresa y la persona trabajadora no está sujeto a control por parte de lanbide pero es que además decía usted

por lo que no se exige a las entidades la justificación de los costes por qué no se exige señora artolazabal a las entidades la justificación de los costes

le parece a usted normal señora artolazabal subvencionar con dinero público que no se controla porque para este gobierno los centros de formación son los responsables

funciones y de la retribución del personal contratado y la única relación de lanbide es con las entidades y centros y nunca con sus profesionales

ni grandes campañas para controlar ese fraude señora artolazabal según usted misma

o detecten en su contratación o remuneración algún problema

instituciones competentes en esta materia quiere decir usted señora artolazabal que lanbide no es competente en esta materia

así entiende usted señora artolazabal la calidad de la formación para el empleo considera apropiado usted

gestionados mediante la ley de subvenciones son los formadores y las formadoras quienes deben investigar el convenio de las empresas para poder negociar su salario

pero es que además entre las funciones docentes no solo se debe contemplar la impartición de los cursos sino que hay que tener en cuenta la preparación la programación la elaboración y selección de materiales sobre la elaboración de exámenes e informes sin embargo y cito literal

en los módulos económicos que sirven para establecer el importe con el que lanbide financiará

no se diferencian conceptos como pago por hora lectiva ni por hora dedicada a la preparación de clases o material didáctico por qué ha decidido usted señora artolazabal que no se especifiquen conceptos

cuando se realizan las acciones formativas con fondos públicos o es que ni le importan no cree usted que eso influye negativamente en la calidad del empleo de la formación que se imparte señora artolazabal nosotros evidentemente no entendemos cómo su departamento

da la calidad de formación para el empleo

nosotros lo tenemos claro a través de un cuerpo de formadores acreditado estructurado y reconocido y usted señora artolazabal

yo señor bollain creo que ha vertido una serie de acusaciones que desde luego no le consiento porque desde luego acusarme que del dinero público no se controla de que facilito el fraude

desde luego creo que no es ni cierto ni es verdad para nosotros tan importante como para usted es la calidad y la formación que prestamos y lo que sí que a nosotros nos importa y sí que además así lo venimos haciendo es un control

de los espacios técnicos de la profesionalidad de los formadores de sus curriculum para que puedan seguir impartiendo trabajando en función también de la inserción de esos cursos de cara a

las condiciones que tienen pero también le tengo que aclarar señor bollain

no estamos ni en un régimen de concierto ni en un régimen de pago delegado que nosotros estamos en un régimen de subvenciones sujeto a la normativa y que lo que nosotros sí que hacemos es a la hora de proponer la formación que se tiene que impartir

es hacer comprobaciones de los convenios y según el convenio que exista se financian

horas lectivas diferenciando si son centros privados o si son también centros concertados pero esto parece que no le parece suficiente porque estamos sujetos al régimen de subvenciones eso es algo que le tiene que quedar claro y además esto es algo que se lleva ya realizando desde que era el inem

formó lanbide más de treinta millónes de euros

relacionadas con la formación profesional para el empleo más de seis millónes también destinados a la formación para el empleo en el ámbito de los servicios públicos y por tanto señor bollain

que reconociera que la formación que se realiza en lanbide es una formación que se vigila que se controla y si no es así

venga un día a mi despacho y dígame cuáles son los cursos en los que se están produciendo estas situaciones para que se produzcan las mejoras que tenemos que llevar adelante

yo sí que confío en la profesionalidad de los trabajadores de lanbide creo

un trabajo a veces muy cuestionado y que creo que vela por la calidad de la formación que desde lanbide se está prestando y además esto nos tiene que llevar también a saber cuál es de alguna forma la impresión que tanto los profesionales que yo también he preguntado en relación a la interpelación que ustedes nos hacían si existía algún problema en concreto con los formadores con el personal docente y me han contestado que no tenemos

de que tengamos un problema con los formadores sí que también me gustaría que se reconociera la calidad que se imparte y esto sí que lo hacen los propios usuarios de la formación y también los profesionales que la imparten

de un trabajo adecuado tanto en el diseño en la planificación de los contenidos y la exigencia de que los profesionales que son

realizan y tienen unos perfiles suficientemente adecuados para poder llevar adelante esas formaciones cuando finalizan las actividades de formación el personal técnico de lanbide realiza una visita de acción formativa para verificar las condiciones del centro y pasan a las participantes la encuesta final para solicitar una valoración global del curso

para la evaluación de la calidad de las acciones formativas y además si se detecta alguna deficiencia se notifica al centro y se hace constar en la evaluación del curso por tanto señor bollain creo que tenemos que ser rigurosos a la hora de plantear acciones de mejora nosotros sí que

no traslade la sensación de que no hay control en lanbide porque no es cierto sí que estamos

teniendo en cuenta la opinión del personal docente y de los tutores sobre el desarrollo de los cursos y creo que flaco favor hacemos a lanbide y a la formación si generamos este ala de dudas sobre la calidad de la misma mila esker

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi hoy estamos aquí porque desde el diecinueve de marzo señora artolazabal

lamentable que no me esté escuchando sin información sin tener en cuenta las orientaciones de la agencia vasca de protección de datos incumpliendo sin complejos el reglamento europeo que hoy

el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho da comienzo la segunda fase del proyecto de identificación biométrica en lanbide

de al menos treinta personas usuarias al día enviando mailing informativos en el caso de no llegar a esa cuota

en el desarrollo de la instrucción correspondiente y yo desde la preocupación

le pregunto señora artolazabal cuáles son las medidas que está adoptando el gobierno

pero además aprovecho para preguntarle también si hace suyas las palabras de la señora arregi el treinta de abril del dos mil quince

a futuro podría ser una forma para identificarnos ante la administración pero se pueden y se deben dar pasos previos para asegurarnos de su buen funcionamiento

que no podemos olvidar que en su totalidad es un colectivo que merece especial protección y si considera

y al mismo tiempo poner en marcha una serie de medidas piloto que a día de hoy no tienen el respaldo que debiera

y por responsabilidad señora artolazabal preocupada me quedo no sé si tiene usted la costumbre de ver las comparecencias que se producen este parlamento pero el pasado quince de marzo la señora

haciendo alusión al dictamen dos mil doce del grupo de trabajo del artículo veintinueve del reglamento europeo

en relación a los posibles riesgos del uso de la huella digital como mecanismo de identificación primero

conducir a una disminución gradual de los derechos de las ciudadanas dos

invasivo tres el uso de la huella o cualquier otra interferencia en la protección de datos en una sociedad democrática podrá utilizarse para proteger un interés público importante cuatro el uso de la huella nunca podrá tener lugar sin el consentimiento de las personas sin

explícita decía la señora uria que no sirve de nada que sea tácito que no se considere libre si es obligatoria su aceptación

en el uso de medidas como la de la huella además se considera que el consentimiento es más débil si hay un desequilibrio entre empleador y empleado por lo que es indispensable que haya garantías suficientes de que este consentimiento es realmente libre también nos decía

o personas con discapacidad y todo ello atendiendo a tres riesgos fundamentales el primero la usurpación de la identidad la identificación y la autentificación

la violación de estos datos y yo le pregunto qué dice usted a todo esto

yo continúo con afirmaciones de la señora uria además de lo anterior nos decía que los datos biométricos son considerados categoría especial de datos personas y en concreto que según el artículo nueve del reglamento que hoy entra en vigor se titula tratamiento de categorías especiales de datos personales los siguientes corresponde al legislador

establecer la base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas con base al artículo cuarenta y siete de dicho reglamento en el caso de categorías especiales de datos categoría como la que ya le he explicado que ocupan estos que hoy abordamos las medidas que se adopten deben estar amparadas en una ley específica en conclusión señora artolazabal

las normas establecen que el tratamiento de este tipo de categorías especiales tienen que tener una especial regulación y dónde está le pregunto

y cualquiera que no esté escuchando desde fuera desde el pasado diecinueve de marzo en un cálculo grueso a treinta personas por día diez oficinas en cuarenta días tenemos a más

sin una regulación que lo respalde eso significa señora artolazabal aunque usted no tenga a bien hacerme caso que a más de diez mil personas se les ha aplicado una medida sin solventar la inseguridad jurídica

informado y voluntario puede usted demostrarme las garantías yo a estas alturas lo dudo y mucho

dudosa la voluntariedad entre la relación entre empleado y empleador qué decir entre una persona perceptora de rgi o una persona desempleada y lanbide porque acaso son ustedes conscientes de los riesgos a los que están sometiendo a las más de doscientos setenta mil personas

son conscientes de que están actuando como mínimo muy al límite de la normativa yo por si acaso

que como máxima autoridad en la materia usted no va a cuestionar unas cuantas cosas la primera

ni revocar es única para todos los servicios y en caso de que algo ocurra se compromete la identificación de la persona en todos los servicios para el resto

que hay posibilidades muy limitadas de modificación de la medida y si como en el caso de lanbide se aplica tomando las diez huellas dactilares señora artolazabal me atrevo a decir que eso es prácticamente

es cómoda sí pero no mucho más segura que otras medidas cuarto necesaria y obligatoria una evaluación del impacto sobre el derecho fundamental de la protección de datos porque lo que protege la normativa es a las personas y para ello

a lo loco y por último que el almacenamiento de las medidas de identificación biométrica es una cuestión muy crítica ante esto

quien las guarde cosa que por supuesto no pasa en lanbide

es una empresa magnifica muy valiosa pero no tiene lugar ni papel en ser garante en el entramado público ni en la valoración de las conductas de las administraciones públicas

ley sin informe de impactos sin evaluación de riesgos sin información y con carteles que como este

que ustedes esto de la huella ya lo tienen hecho afirman que va a ser obligatorio y les da igual lo que diga el parlamento lo que digan los colectivos sociales y lo más importante lo que diga la agencia vasca de protección de datos lo afirman hasta el punto

el señor belandia que se llevará hasta las últimas consecuencias y yo me pregunto esto es una amenaza le da igual la ley o también me va a hablar

para abordar y acompañar a quienes están en situación de desempleo y por lo tanto en la precariedad de quien tiene al menos

eso es no tener el más mínimo respeto a los derechos de la ciudadanía a la que usted también se debe aunque en la obsesión por ser policía de la pobreza a veces se le olvide

y responde a la incorporación de nuevas tecnologías en la mejora de la gestión de las diferentes organizaciones y administraciones

en los servicios de lanbide no solo es para las personas desempleadas es para todos los servicios prestados en materia de inclusión formación para el empleo acompañamiento además

el nuevo reglamento general de protección de datos llega hoy viernes a los países de la unión europea para poner al día la legislación europea sobre la materia buscando dar a la persona usuaria una participación activa sobre quién tiene o qué hacer con sus datos la regulación pondrá al día la anterior directiva de mil novecientos noventa y cinco que nació en una europa sin redes sociales y con un porcentaje de usuarios de internet muy inferior al del dos mil dieciocho

el gobierno vasco ya ha comenzado a adoptar las medidas que requiere la aplicación del reglamento al que usted se refiere en materia de protección de datos la normativa autonómica actualmente vigente es la prevista en la ley del parlamento vasco dos barra dos mil cuatro

ciertas cuestiones respecto del marco normativo que resulta de aplicación en la comunidad autonomía de euskadi

dos mil dieciséis barra seiscientos setenta y nueve del veintisiete de abril resulta de directa aplicación

a pesar de su característica de aplicabilidad directa en la práctica puede exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación y en este sentido el legislador estatal ha considerado que la adaptación al reglamento general de protección de datos según establece el artículo noventa y nueve

un proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal que tiene por objetos según su artículo primero adaptar el ordenamiento jurídico español al reglamento de la unión europea

sus disposiciones este escenario ha determinado que el gobierno vasco a día de hoy únicamente haya adoptado medidas de corte organizativo que acompañen a las previsiones citadas a la espera de la definitiva adaptación del ordenamiento jurídico estatal al reglamento europeo así en el boletín oficial del país vasco se publicó el decreto siete barra dos mil dieciocho de diez de abril que adapta

quedando atribuido al departamento de gobernanza pública y autogobierno la obtenencia de la nueva figura del delegado de protección de datos asimismo ayer también se publicó

del decreto de estructura orgánica del citado departamento que crea y regula los aspectos básicos de dicha figura del delegado de protección de datos por otra parte se elabora para su aprobación por parte del consejo de gobierno un acuerdo que

organizativamente los diversos roles para la protección de datos que determine el reglamento europeo también lanbide designará una persona responsable en esta área

la ley treinta y nueve barra dos mil quince de uno de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

esos procedimientos según la ley han de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y redundar en una necesaria simplificación administrativa para la ciudadanía

de las personas interesadas para que estas puedan válidamente realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo en el caso de las personas físicas los datos identificativos que son objetos de comprobación son el nombre y apellidos coincidentes con su dni tarjeta de identificación tie o pasaporte

resultaba esencial habilitar un sistema simple rápido y seguro de identificación autentificación y de firma de ciudadanía por ello se analiza la disposición de sistemas de identificación y firma electrónica validos según la normativa vigente y que permitan ejercer mejor los derechos

cumplimiento de las obligaciones ciudadanas en la actualidad los sistemas basados en reconocimiento biométrico

ello en todos los campos administrativos deportivos culturales educativos laborales asistenciales la biometría es un método automático de reconocimiento de personas basado como usted dice en características físicas o de comportamientos únicos que permite que una persona se identifique y autentifique con base

que son únicos y específicos para él o para ella el funcionamiento es fácil y sencillo y permite la acreditación de la identidad de manera rápida eficiente y segura siendo la identificación y la firma electrónica elementos inexcusables en la implantación de los servicios electrónicos el gobierno vasco ha de dar cobertura a los mismos a fin de que las personas usuarias de los servicios puedan utilizarlos con seguridad y garantías plenas

que permitan a la ciudadanía y a las empresas relacionarse entre sí y con las administraciones accediendo a los servicios públicos con garantía de integridad y confidencialidad el gobierno vasco y las diputaciones a través de sus respectivas sociedades informáticas

totalmente pública capital cien por ciento público no es privada señora guanche

actúa como un sistema propio y común de identificación y firma electrónica y en este

más seguros basados en la captación de datos biométricos la magnitud de las solicitudes gestionadas por lanbide y el volumen de personas atendidas presencialmente y en otras entidades colaboradoras de la prestación de los servicios de empleo obliga a implantar procesos de digitalización

esenciales y reiterados por procedimientos y mecanismos más eficaces que permitan a las personas usuarias del organismo recibir todos los servicios de forma óptima así al igual que otras administraciones empresas u organizaciones lanbide va a establecer la identificación digital mediante datos biométricos previa inserción y registro

todas las personas interesadas están siendo informadas y serán informadas con anterioridad del nuevo método de identificación de su significado de la fecha de efectos y garantías así como de los medios puestos a su alcance para realizar de forma ordenada la implantación del nuevo modelo en cuanto a la protección de datos cabe indicar que los datos biométricos tienen la consideración de datos de carácter personal

de protección de datos de carácter personal además como usted indica esta materia se ve afectada por el nuevo reglamento de protección de datos que entra hoy en vigor y que

considerados datos de categoría especial el nuevo sistema de identificación cumple las previsiones legales en materia de protección de datos de carácter personal cumple las previsiones legales toda vez que los datos tratados adecuados a los fines para los que se recaban y que el proceso contará con el consentimiento previo y explícito actualmente la recogida de los datos biométricos para la identificación

en las oficinas de lanbide y hemos propuesto que en la disposición adicional séptima de la modificación del apartado tres del artículo dos de la ley

se incluya estos efectos que lanbide utilice sistemas biométricos

atendiendo a las especificaciones derivadas de la legislación de protección de datos los datos biométricos obtenidos se registrarán en el fichero de identidades de que será el responsable del mismo conforme a lo dispuesto en la ley orgánica quince barra mil novecientos noventa y nueve con fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete

suscribieron un convenio para la puesta en marcha de medios de identificación electrónicos basados en la captación de datos biométricos

para la expedición de medidas de identificación digital y electrónica

adaptará las medidas apropiadas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos determinados en el reglamento europeo mila esker eskerrik asko

bueno señora artolazabal primero eskerrik asko por la clase

porque usted no solo no me ha respondido insisto sino que parece que no ha hecho los suyos y parece que insinúa que no

y yo vuelvo a preguntar cuáles son las medidas que se están adoptando para cumplir

con el reglamento europeo que hoy entra en vigor y yo le digo no hay medidas suficientes y también le digo no salgo

usted está surfeando sin complejos la legislación europea y haciendo oídos sordos

la señora uria nos decía que a la agencia oficialmente le había llegado una petición de opinión

en la comunicación a la agencia se le anunciaba que tenían intención de iniciar un procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general a lo que la agencia le contestó

esté en vigor sin perjuicio por supuesto de las consultas que se puedan atender

que no ha pasado por este parlamento también nos decía la señora uria que no parece voy a citar textual no parece que el proceso vaya a contar con el consentimiento explícito que establece el reglamento ya que la orden emitida por el viceconsejero se deduce

ya no se deduce ya está claro que lo quieren hacer obligatorio no salimos de nuestro asombro

a si lo están considerando desde una perspectiva ética o no si no que usted no está cumpliendo los requisitos el artículo treinta y cinco del reglamento europeo que tengan adaptado más o menos hoy entra en vigor y tienen obligación de cumplirlo dice que tiene usted que presentar un informe de impacto de esta medida dónde está dónde está el análisis de riesgo es consciente de que esto es una

y de que así ya se lo ha informado la agencia vasca de protección de datos este es el gobierno del bien común y la formalidad hay muchos casos como bien decía usted en los que se aplica firma digital e identificación

no lo tiene legalidad proporción adecuación

ponderando la situación concreta ponderando el por qué y el para qué en el caso de las personas desempleadas hay que ser especialmente cuidadosa por la vulnerabilidad de los datos y a día de hoy en lanbide con este documento señora artolazabal que está puesto en su página web no se cumple y no se cumple porque no se puede presumir que el consentimiento se haya otorgado libremente porque además no permite autorizar por separado las distintas operaciones del tratamiento de datos ni que cada persona de su consentimiento para unos documentos y no para otros además se hace depender el derecho de la rgi a la firma de este

por esto usted con lanbide está cometiendo como mínimo una irregularidad además esto no explica que es una facultad de la persona usuaria no informa de qué manera puede ser revocado el derecho finaliza con una cláusula extensiva contraria a derecho

están prestando un cheque en blanco y esto se aplica hoy al igual que su proyecto piloto sin respaldo legal señora artolazabal

manifestamos nosotras aquí y le han puesto unas cuantas reclamaciones muchos colectivos sociales en estos días ante la agencia vasca de protección de datos

recordarle recordarle que es lo más importante de toda esta interpelación de hoy

que para garantizar que el consentimiento se haya dado libremente este no debe constituir un fundamento jurídico válido

entre el interesado y el responsable del tratamiento aquí lo voy a dejar usted sabrá la responsabilidad que tiene

a este parlamento y desde luego creo que le hemos dado todos los detalles

que entendiera los términos en los que la huella se está implantando en estas oficinas de forma voluntaria para que en el momento que esta cámara estime oportuno en la propuesta de modificación de renta de garantía de ingresos que hemos presentado

de ese artículo que le cito de mi primera intervención de lanbide sea un requisito que tenga que cumplir las personas que se

las personas que se están acercando a lanbide lo están haciendo de una forma totalmente normalizada donde se les está

los requisitos cuáles son las consecuencias que tiene de llevar adelante consentimiento informado y que por tanto lo están haciendo de una forma totalmente normalizada

actualización de los recursos y la adaptación de las nuevas tecnologías y es lo que está haciendo lanbide

éticas ni de cuestiones de otra índole nosotros estamos aplicando las nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la organización y prestar un servicio de mayor calidad

sin ningún tipo de problema en un montón de organizaciones y administraciones precisamente los componentes de esta cámara cuando formaron parte de la delegación parlamentaria que fue

mediante este sistema y no pasó nada y también se les ha puesto de cara a acceder al garaje de este parlamento la identificación de la huella digital y tampoco pasa nada por tanto se trata señora guanche si me permite

en el turno de mi palabra de una herramienta moderna

que debe ser utilizado con las garantías suficientes por supuesto que estamos en ello señora guanche no me cabe ninguna duda de que nuestros servicios y los servicios del gobierno están trabajando

a todas las iniciativas que este gobierno pone en marcha que respete la privacidad de las personas

y cumpliendo con la legislación aplicable insisto la exigencia de este control tiene su base

en la mejora que se incorpora a las posibilidades del uso de la

una ventaja adicional los usuarios que se acercan a lanbide no lo vea como otra cuestión que tenga que ver con otra serie de medidas esto simplemente es una herramienta moderna que va a ayudar a la gente a que se relacione de una forma más ágil y con mayor calidad con nosotros somos conscientes de la categoría de protección especial que hay que otorgar a los datos que manejamos también la misma normativa habla de dos datos

que tienen que tener los datos sanitarios los datos relativos a la asistencia social y desde la responsabilidad que tenemos

desde el primer momento una especial atención a la definición de todo el proceso

las administraciones públicas estamos inmersas como le digo en un área de modernización y mejora adaptando las fórmulas de gestión fórmulas digitales y telemáticas que hacen que los servicios que prestamos sean más eficientes ágiles y en base a parámetros de calidad tenemos que simplificar y para eso lo estamos haciendo y agilizar trámites que puedan realizarse de manera telemática y para eso estamos dando una respuesta más rápida y adecuada utilizando estas nuevas fórmulas de relación y de iniciativas telemáticas

su solicitud cobra especial importancia y para ello también estos datos biométricos van a valer teniendo en cuenta el número de personas que se pueden beneficiar de esta agilidad

además mayor sentido una vez que el avance tecnológico contribuye a la mejor gestión

y tenemos claro que el reglamento europeo de protección de datos será de obligado cumplimiento a partir de hoy y este

estima que su uso ha de circunscribirse a las áreas de protección social

o razones de interés público y también para un mejor control y esta exigencia se hará en todo caso respetando los derechos de la ciudadanía y cumpliendo escrupulosamente

buenos días gracias señora presidenta señores consejeros señor arriola dice ura en su página web que desde mil novecientos noventa y ocho la agencia vasca del agua

la agencia vasca del agua lleva a cabo un seguimiento del estado de las aguas de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario en vitoria con el objetivo principal de conocer la evolución de la concentración de nitratos y determinar el grado de eficacia de las medidas implantadas cuyos resultados se publican anualmente

a la contaminación por nitratos de la masa de aguas de vitoria refleja un incremento significativo

de la mayoría de los puntos de control respecto a los valores de los años anteriores sigue diciendo el informe que el incremento generalizado

parece estar condicionado por el régimen de precipitaciones del año dos mil diecisiete sobre todo en el mes de diciembre sorprende esta justificación y especialmente en vitoria donde lo más normal es que

controles bimestrales y trimestrales en sus puntos de evaluación pero es que el propio informe también dice que las analíticas realizadas en los

respecto al año anterior siete sobrepasan el valor de cincuenta miligramos litro ocho se encuentran

y nuestra pregunta es qué valoración hace señor consejero de este llamativo repunte de nitratos en la masa de agua subterránea de la zona vulnerable de vitoria

pero bueno aclararle algunos conceptos y compartir algunas cuestiones creo que compartimos que la contaminación por nitratos es uno de los problemas más serios

y sabemos que tiene su origen en la intensa actividad agrícola que

llanada alavesa es por lo que la aplicación de la normativa europea

y se desarrollaron en ellos los correspondientes planes y de control este es el caso de la unidad hidrogeológica de vitoria gasteiz con los tres sectores que usted ha comentado y efectivamente en el informe anual de seguimiento de la zona vulnerable del diecisiete

y como usted decía el propio documento expone que el incremento que se ha producido viene derivado por la consecuencia de que se ha producido durante los meses de noviembre y diciembre un registro anormalmente alto de precipitaciones

pero también lo cierto es que el incremento de precipitaciones de este pasado mes de diciembre noviembre y diciembre ha sido un ochenta por ciento superior a la media

directa relación entre el régimen de precipitaciones y la concentración de nitratos de forma que los contenidos más altos de estos se producen en épocas de intensas lluvias

al proceso de lavado y arrastre del acuífero como consecuencia

existente en las tierras esto es lo que aparece en el informe de ura

durante los días previos al muestreo de diciembre entre el veinticuatro de noviembre y el dieciséis de diciembre se recogen en la estación meteorológica de foronda una precipitación de ciento treinta milímetros

y esto es lo que ha ocurrido lo cierto es que hay que poner

le he comentado pero sin dejar de hacer el seguimiento oportuno

seguir haciendo permanentemente de este importante acuífero eskerrik asko

de declaración de zonas vulnerables atendiendo a la normativa europea y al real decreto del gobierno de españa y en dos mil se publicó el plan de actuación sobre las zonas

de nitratos que aquel año cuando se procedió a la aplicación de la zona vulnerable de vitoria

de actuación usted cree que este repunte

están pensando ustedes en hacer una evaluación de los planes de actuación también de las zonas vulnerables han hecho catas en otros puntos próximos hay

ampliar el campo de actuación de vigilancia señor consejero solo las lluvias me parece un argumento muy simple creoque estamos hablando

obligación de su gobierno el controlar y estar atento a estas evoluciones que pasan desde el dos mil ocho hasta este año no ha habido un repunte a mí me parece que además de las lluvias que como lo digo es algo habitual en esta comunidad autónoma

en algo más y eso es lo que yo le quiero preguntar si está pensando en actualizar los planes de actuación en evaluar las zonas del entorno de estas zonas declaradas vulnerables para poder tener algunos elementos de juicio más

que concluye que pese a este repunte significativo del diecisiete la serie histórica de los contenidos de nitrato en el entorno de la zona

en la mayoría de los puntos de control y esta es una constatación científica ahora es cierto que

satisface plenamente al departamento y por eso vamos a continuar con el seguimiento minucioso del control

para tratar de reducir al mínimo posible su contaminación esto es algo que no compete solamente a ura que hace las labores de control del agua

al departamento de agricultura que es el competente en los controles del uso de los fertilizantes y que lógicamente lo tiene que hacer y por lo tanto

eso suponga también una menor afección al acuífero

me decía usted si estamos analizando el cambiar o actualizar los planes de control lógicamente hay una parte que tiene que ver con la

de medio ambiente y por consejo de ura sí que estamos analizando la ampliación de la zona de vulnerabilidad

la diputación de bizkaia llegó a un acuerdo con la diputación de gipuzkoa para poder verter las basuras guipuzcoanas

diez años después tenemos que ambas diputaciones están buscando un nuevo acuerdo en esta ocasión para verter las basuras en un vertedero de mallabia han pasado más de diez años y no hemos avanzado yo diría que en el tema de la gestión de residuos urbanos estamos retrocediendo

a potenciar el reciclaje el compostaje y la recogida selectiva

al parlamento fue a su departamento para ver si iban a asumir la competencia que tiene el gobierno en la coordinación y la planificación de las políticas en materias de residuos urbanos y usted me dijo que eso era competencia

y yo le pregunto viendo el desaguisado en el que se está convirtiendo esta cuestión sigue pensando que el gobierno vasco no tiene que hacer ninguna labor de coordinación en materia de residuos urbanos

gracias señora presidenta señor becerra permítame en primer lugar

de la empresa betearte en mallabia solo está habilitado para el depósito de residuos industriales inertes esta empresa dispone de una autorización ambiental integrada para el vertido de residuos

que como sabe son aquellos que no implican riesgo para la salud una categoría que engloba a los residuos industriales inertes pero también a los residuos urbanos o municipales de construcción o demolición

valorizables la empresa se había especializado en la gestión de

pero solicitó la inclusión en su autorización ambiental de un nuevo código de residuos en este caso urbanos

hizo las comprobaciones oportunas y resolvió que la recepción de residuos de origen domestico no implicaba una modificación sustancial de la autorización en vigor bien

sabe usted perfectamente qué competencias corresponden al gobierno vasco en esta materia que son la elaboración

y también la definición de los requisitos técnicos para la ubicación instalación y explotación

en el ejercicio de esta competencia se hacen las autorizaciones ambientales emitidas para las infraestructuras de gestión previstas en los territorios históricos

a quienes corresponde entre otras cuestiones el desarrollo de la planificación

a través de los correspondientes pales forales así como el impulso

señor consejero usted me ha leído las competencias en materia de gestión de residuos urbanos pero se le ha olvidado leer más arriba laley de general de medio ambiente dice

el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general y aquí la cuestión es que la renuncia del gobierno a coordinar está

en dos aspectos fundamentales el primero que no se está cumpliendo las leyes y el segundo que se están utilizando los recursos públicos de manera muy poco eficiente en efecto la ley no se está cumpliendo porque tanto bizkaia como gipuzkoa tienen planes de residuos que están caducados ahora mismo

utilizar infraestructuras de otros territorios por lo tanto se está incumpliendo la ley pero además ese vertedero al que usted se refiere tuvo un incendio

este grupo parlamentario esun vertedero que posiblemente no está preparado por mucho que las autorizaciones así lo digan no está preparado para admitir residuos urbanos y se está incumpliendo la ley con la pasividad y con la complicidad de su gobierno

de forma muy poco eficiente porque si como parece ser

que esta opción da solución a la totalidad del excedente de la fracción resto

esto significa que la incineradora de zubieta no es necesaria y si no es necesaria si no es necesaria la incineradora de zubieta porque zabalgarbi tiene capacidad para coger todos los residuos

y que por lo tanto no son ni compostables ni reciclables entonces si la incineradora no es necesaria es competencia del gobierno vasco y le vuelvo a leer sus competencias

sólidos urbanos es decir ustedes tienen que decir cuántas incineradoras y cuántos vertederos necesita este país para no estar malgastando el dinero público en infraestructuras innecesarias y a día de hoy nos vamos a gastar mil millónes de euros

incineradora que con los datos en la mano no es necesaria y además ustedes están incumpliendo las promesas electorales que su grupo político hizo en dos mil quince cuando el señor

decisión de recuperar el proyecto incineradora había que realizar previamente un estudio que justificase su construcción y que era bueno lograr acuerdos para crear infraestructuras

eficiente es decir no solamente no necesitamos la incineradora sino que ustedes prometieron hacer

o sea que vamos a ver queríamos llegar a esto la incineradora de zubieta no es necesaria a esto queríamos llegar parece no sé

con esta pregunta que me hace usted será necesaria porque o no será necesaria porque lo diga usted me imagino que esa será la cuestión en última instancia como estamos hablando de resolver un

un problema puntual y para eso están hablando las diputaciones forales de gipuzkoa y de bizkaia un problema que supone

y se analiza la posibilidad de o bien proceder al vertido

no entiendo que esta cuestión puntual sea algo objeto de la competencia planificación marco de la gestión

a nivel de euskadi que compete a este departamento la función que nos compete como gobierno vasco no es otra en estos momentos que la de respetar ese ejercicio de diálogo y negociación

y eso no solo por respeto a sus competencias sino porque como dice la sabiduría popular

ahora bien si ambas partes o alguna de ellas

no tenga ninguna duda de que haremos mejores oficios para buscar la solución que sea posible

del órgano de coordinación de residuos urbanos de euskadi y señor becerra la cuestión de los residuos

pero en los últimos tiempos sí se está avanzando no es algo que sea nuevo como le decía viene de hace muchos años pero afortunadamente esto va a estar resuelto en el plazo de un año o poco más

de viaje por navarra cantabria o francia nadie planteaba que nuestro departamento tenía que actuar haciendo uso de sus labores de coordinación entonces parece que habla usted de turismo

gracias señora presidenta buenos días a todos

puede parecer que quizás este sea un tema muy puntual para traerlo a este pleno pero créame que para los padres

para los niños y las niñas de ese centro es un tema fundamental un tema fundamental por muchos motivos que explicaré a continuación fundamental por el tiempo que llevan esperando

fundamental para que vean que las instituciones que el gobierno vasco atendemos sus demandas y estaremos atentos a su respuesta y esta interpelación nos permitirá en caso de que no fuera satisfactoria presentar una moción para que la cámara

en este momento en el colegio luis briñas estudian cuatrocientos cincuenta

es un edificio que fue diseñado por el arquitecto pedro ispizua que tiene un gran valor patrimonial pero que ese mismo valor patrimonial que es indudablemente

pues tiene sus limitaciones por ejemplo no se pueden hacer anexos que rompan la estructura del edificio y ello obligó llevar a cabo un patio cubierto tuviera que ser en estructura semienterrada ese patio cubierto era una

porque no tener una cubierta les obligaba a que cuando llovía

he hecho al centro y que han llegado incluso hasta los noventa decibelios en sus picos máximos tal y como reflejaba un informe de salud

por ello en el año dos mil trece para el presupuesto de dos mil catorce presentamos y se aprobó una enmienda solicitándose

presupuestaria para que se hiciese este patio cubierto un patio que como digo permitiese a los niños y niñas utilizarlo

iba a ser un patio se convirtió en una pista polideportiva cubierta cuyas obras

y que dieron lugar a la creación de una comisión la comisión aterpe para

primero que pudieron comprobar esta comisión es que carecían de baños y vestuarios lo cual señora consejera he de decirle que es chocante cuanto menos lo normal es que una pista deportiva cuente con un espacio donde se puedan cambiar y donde se puedan duchar los niños

lo normal es que pudiera contar con unos baños porque usted sabe señora consejera el camino que tienen que recorrer desde que están en ese patio

yo sí lo sé porque he estado allí y ciertamente es un camino

o el recreo por ello en esta cámara se presentó una iniciativa que se aprobó el dieciséis de octubre del dos mil diecisiete en la comisión de educación en la que se instaba al gobierno vasco a dotar al proyecto de esos y vestuarios pero una vez más en el gobierno lo que diga este parlamento se tiene poco en cuenta también la cuestión se llevó al ararteko y no solamente parece que no nos hacen caso al parlamento vasco sino que también el ararteko dice literalmente que hubo de hacer

hasta que obtuvo una contestación y así el veintiocho de marzo de este año dos mil dieciocho por fin han recibido en la oficina de la institución del ararteko un informe del director de infraestructuras recursos y tecnologías en el que se señala que la normativa de contratación no permitía una modificación contractual y que por lo tanto

la ubicación más adecuada de baños y vestuarios se procedería a la redacción de un nuevo proyecto de ejecución para la posterior licitación de la correspondiente obra la verdad es que vista la obra vista in situ

de esos baños y vestuarios parece muy clara lo que ya no tenemos tan claro es visto el ritmo de ejecución de los proyectos por este gobierno visto

de ejecución y lo que han tenido que esperar para que este proyecto vea la luz pues realmente lo que no sabemos es en qué fecha esos baños y vestuarios como digo

cuestiones que le vamos a plantear señora consejera cuánto tiempo va a tener que pasar hasta que se redacte ese proyecto de ejecución

y creo que la respuesta también debiera serlo y hay otra duda que surge porque el ayuntamiento ha dicho que no va a recepcionar

el tema de los baños y vestuarios es más importante aún las deficiencias que han sido contempladas en el proyecto que han impedido

y que pone en peligro que en septiembre este patio cubierto pueda ser utilizado por los niños y niñas del colegio luis briñas

de deficiencias y sobre todo de problemas de seguridad que fueron comunicadas al gobierno vasco y otra de las cuestiones que le quiero plantear señora consejera

le parece normal que sea la comisión una comisión que se crea en un colegio

de la misma porque realmente es verdad y ahora me referiré a él que su departamento

porque desde la propia comisión se le comunican cuáles son esos defectos y deficiencias van allí y una vez allí elaboran el informe

concretamente desde el responsable de obras instalaciones y mantenimiento se realiza el informe al que me refería

cubierta problemas y deficiencias que se pueden ver a simple vista que ni tan siquiera hay que ser un técnico en la materia para darse cuenta de ellas porque créanme yo

sin ser ninguna experta en construcciones y obras las pude ver perfectamente y deficiencias además que son importantes sobre todo

porque muchas de esas deficiencias comprometen la propia seguridad de la infraestructura y me explicaré el revestimiento de la fachada y las puertas están hechas de material cortante si uno pasa las manos por dichas puertas se corta los dedos fijo usted de verdad cree que hay un niño y una niña se le puede decir no toques la puerta y no la va a tocar

sido colocadas nunca otra cuestión es el muro de las pendientes

un muro que era fácilmente escalable como se le dijo

se colocó una malla una red como las que están en los campos de fútbol igual que si uno se apoya en la misma puede vencer perfectamente

la rompe esa es toda la seguridad que se le va a dar a la infraestructura esa misma malla esa misma red también es la que se ha puesto en todo el perímetro del muro que bordea a la parte superior del edificio

a la calle y en qué vamos a confiar en que le vamos a decir a los niños que no pueden escalar que no pueden cortar la red que no se pueden apoyar en la misma

de verdad la seguridad del edificio la vamos a dejar en eso en el cumplimiento de los niños o no debiéramos poner los medios para que eso

menores que por no extenderme no las voy a decir aquí pero a pesar de este informe a pesar de los problemas de seguridad yo le quiero preguntar porque es lo que ha llegado a nuestros oídos el gobierno vasco ha recepcionado la obra

pero la ha recepcionado y estas deficiencias ha dicho que van a ser resueltas no

la solución de esas deficiencias yo quiero preguntarle si es eso así señora consejera si se va a tener que pagar a otra empresa diferente para que solucione las deficiencias que hizo la empresa anterior y que no solucionó y que de haber hecho un seguimiento correcto

es esta la forma de actuar del gobierno vasco la forma habitual de actuar

por eso nosotros lo que le queremos preguntar es cómo y cuándo se van a resolver esas deficiencias se van a resolver antes de septiembre cuáles son los propósitos de su gobierno en relación a la solución de estos problemas de seguridad
que se han visto en el colegio luis briñas de santutxu en bilbao eskerrik asko llanos anderea uriarte anderea zurea da hitza

respecto a las necesidades de escolarización el programa preveía inicialmente más de sesenta y dos actuaciones de ampliación adecuación y creación de nuevos centros educativos para hacer frente a la demanda de nuevas plazas escolares en el apartado de obras de reforma mejora de adecuación a la normativa que

no solo en su vertiente conservación sino en cuanto a su adecuación a las exigencias que los nuevos retos educativos asistenciales y de servicios demandan a la escuela hace especial hincapié en los trabajos que permitan una correcta accesibilidad a los centros de enseñanza

y que permite gestionar con la mayor eficiencia posible la inversión destinada al mantenimiento y mejora de infraestructuras de titularidad municipal el programa ha apostado por la convocatoria denominada udal laguntza

y desarrollo del programa estaltzen para la cobertura de patios escolares pero además de todo esto hemos de subrayar que el plan de infraestructuras fue concebido como ya he señalado al inicio de mi intervención

y compromisos medibles y flexibles en este sentido es importante destacar

en concreto más de cuarenta y tres actuaciones adicionales centrándonos en el caso que nos ha traído usted a esta cámara la definición del proyecto y la ejecución de la obra de la nueva pista cubierta del ceip luis briñas objeto de su pregunta

el objeto del citado proyecto era dotar al centro educativo de un espacio de juegos cubierto

respondiendo a la reivindicación del centro como es conocido

encajonado entre calles y la haurreskola municipal lo que nos ha condicionado una posible ampliación del actual recinto escolar por otro lado el edificio

está sujeto a una protección especial por el plan general de ordenación urbana de bilbao por ser un exponente de la arquitectura racionalista

desde el departamento junto con el ayuntamiento de bilbao se propone la ejecución de la pista de juegos de forma semisoterrada con dos cuerpos diferenciados dentro del mismo volumen

zerbitzua emateko para poder iniciar la redacción del proyecto de ejecución fue necesaria la puesta en disposición del terreno anexo

la tramitación de un estudio de detalle y finalmente la aprobación de la actuación en la comisión de patrimonio del ayuntamiento de bilbao todo ello ha supuesto un trabajo adicional

y quiero destacar la colaboración del ayuntamiento de bilbao en el desarrollo de estos trámites que como ya he indicado son largos complicados y costosos

deficiencias y subsanaciones tal y como se hace habitualmente

consecuentemente esta actuación con la solución arquitectónica que se ha decidido ha permitido que el colegio luis briñas además de una nueva zona de juegos cubierta cuente con una ampliación adicional del patio superior

obviamente y como cualquier otra actuación de estas características actuaremos técnicamente como proceda en el interés del centro y de nuestros niños y niñas hasieran

señora uriarte yo sí se lo digo con todo el respeto pero me parece una falta de respeto que usted

la contestación de determinadas preguntas que han sido muy claras y se haya dedicado su primera parte a hacernos un publirreportaje

que puede estar muy bien pero que tiene otros instrumentos para hacer esos publirreportajes cuando pide la comparecencia a petición propia

pero no aprovechar una pregunta una interpelación con unas preguntas muy concretas sobre un tema muy concreto y determinado como le digo para no contestar y dedicarse a hacer un publirreportaje y dice usted que es la obra de luís briñas verdad tenía muchas dificultades por eso se tardó tanto en hacer y oiga los padres llevaban demandando esta obra mucho tiempo y le diré

que hay una enmienda metida por un grupo de la oposición a través de mociones de un grupo determinado de la oposición el nuestro tanto en el ayuntamiento de bilbao como aquí

es que lo que queríamos es que este colegio obtuviera un patio cubierto para que los niños no acabaran con sordera jugando

en el centro le voy a decir reuniones como una que no sé si la contarán como reunión con la directora en la que bajó la directora mientras estaban representantes del gobierno vasco se los encontró allí y a propósito de eso se celebró una reunión porque si la directora no llega a bajar mientras estaban viendo las canastas los

si todas las reuniones son como esa dice usted que se realizaban visitas semanales de verdad

porque si realizando visitas semanales no han sido capaces

las graves deficiencias que tiene peor me lo pone

pues vale pero si después de ir en la obra unos técnicos ya le digo que yo que soy licenciada en derecho

veo perfectamente los defectos en construcción oiga de verdad

una malla que le digo que seguridad poca que se ve a simple vista en las pendientes que bajan y alcanzan bastante pendiente

un patio superior que tiene ya le digo tenía un murete y los mismo que lo escalaba un niño y se caía a la pendiente o sea ya de la pendiente la altura que había

y todo así y no le digo otras cosas otras deficiencias que se vieron allí que eran de verdad

pues debían ir pero mirar y ver no sé yo hasta qué punto veían y miraban y no me ha contestado no sé si me lo va a contestar después efectivamente primero fue un patio pero es que

no se podía cubrir por las especificidades del propio edificio que yo se lo he dicho

si el patio se hubiera cubierto arriba en superficie ir al baño es muy fácil y muy rápido

por las características del edificio usted sabe lo que tienen que recorrer los niños es que le invito a que vaya es que le invito a que vaya es que de verdad si un niño tiene urgencia y ya sabemos que los niños lo dejan todo para última hora que no llega al baño que no llega aparte de perderse ya le digo la clase o el recreo

que hacen una pista polideportiva cubierta y hacen una pista polideportiva sin vestuarios pues dónde está la pista la pista deportiva tendrá que llevar

está han dicho que lo van a hacer después de la obra cuándo lo van a hacer es bien fácil en qué plazo

y por último porque me parece no sé

quién ha hecho la obra pero es normal le parece normal

y que las deficiencias en lugar de que las tenga que pagar quien ha hecho la obra reclamárselas a quien ha hecho la obra porque la ha hecho mal en lugar de eso

proyecto que cumple con todas las prescripciones técnicas del código técnico de la edificación en todos sus apartados incluidos los de seguridad y accesibilidad del recinto

puesto que no se trataba de ningún recinto polideportivo si no de un patio de juegos cubierto que una vez ajustada a la parcela tenía una superficie de seiscientos cincuenta metros cuadrados

se concedió la licencia de obras por parte del ayuntamiento de bilbao en la tramitación administrativa de esta licencia en ningún momento el ayuntamiento de bilbao impuso ninguna actuación correctora al proyecto

hubiese supuesto la ejecución de un nuevo proyecto previa rescisión de contrato en vigor y la paralización de las obras de ejecución

tal y como fue explicado por el propio arquitecto director de las obras gonzalo ispizua al consejo escolar del centro con fecha del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho se procede a la recepción de las obras conforme al proyecto aprobado

consistentes en proteger la rampa existente mediante una red de seguridad

por otro tipo de panel y proteger la zona exterior de juegos mediante una red de cuatro metros de altura para evitar la caída de balones al vial circundante

solicitadas se ha procedido a la protección del hueco de las rampas mediante una red de malla de nailon se ha ejecutado un cierre metálico

se cambiarán las chapas metálicas de deployé en la zona del patio y en las puertas por chapa lisa microperforada para garantizar su resistencia frente a golpes y balonazos en la zona de rampas se protegerá con policarbonato y se ha colocado la red de malla de nailon para evitar la caída de balones al vial circundante se trata de un proceso normal

y es una pena utilizar este foro para ellos en relación al mandato parlamentario que usted indica como ya le he explicado

estamos intentando buscar una solución técnica que pueda dotar de esos servicios a la nueva infraestructura pero como hemos reseñado existen condicionantes como la naturaleza cultural del bien o las condiciones arquitectónicas

el centro nos ha remitido una propuesta cuya viabilidad está siendo analizada técnicamente esan dizudan bezala

señora consejera parlamentarios parlamentarias traemos hoy aquí

y muy prioritario a principios de año la organización medicus mundi dijo que en toda españa había

en riesgo de sufrir mutilación genital femenina la cruz roja española nos recordó que la mutilación genital femenina atenta contra dos de los objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplirse antes del año dos mil treinta

la mayoría de las menores que son sometidas a la mutilación genital femenina proceden de nigeria

de mali y de gambia donde hasta el setenta y seis por ciento de las niñas son sometidas a esta práctica

nos queda siempre la duda de saber cuántas de esas dieciocho mil cuatrocientos niñas y adolescentes están en el país vasco

en las últimas noticias que tenemos

la consejería de sanidad nos hablan de unas mil niñas nosotros nos

porque vamos a ver entre el año según el ministerio de sanidad fundamentalmente y de igualdad

entre el año dos mil ocho y dos mil doce habían crecido las niñas en riesgo de sufrir mutilación en

un ciento noventa y ocho coma cincuenta por ciento es decir de cuatrocientos había subido a ochocientos dieciocho casi

y eso fue entre dos mil ocho y dos mil doce qué habrá pasado entre dos mil doce y dos mil dieciocho se calculan unas mil si seguimos la progresión sabiendo que

han aumentado y que han nacido ya niñas y adolescentes aquí

aunque sean solo mil ni una sola debe ser permitida

como el departamento de salud del gobierno vasco se ha puesto en marcha y se ha puesto en marcha siguiendo unas recomendaciones que provienen del grupo interdisciplinar para la prevención y el estudio de las prácticas tradicionales perjudiciales de la universidad autónoma de barcelona que hizo un excelente trabajo y que mediante encuestas

aquí nos pone que son en barcelona norte en el maresme y en algunas comarcas de girona que el noventa coma ocho por ciento de los encuestados que eran personas provenientes de estas áreas afirmaron que en su país se practicaba la mutilación femenina y el porcentaje además aumentó hasta el noventa y ocho coma seis por ciento cuando estamos hablando de personas

y también nos dijo una cosa que es francamente esperanzadora y es que

y algo menos de las mujeres estaban dispuestos a abandonar esa práctica tradicional lo que pasa

de sus culturas de origen cuando volvían y este grupo interdisciplinar de la universidad autónoma de barcelona

venían de un antropólogo kaplan que ya en el año a principio de los años dos

en tratar a estas personas que estaban dispuestas a abandonar la mutilación genital femenina y llegar a acuerdos

nuestro departamento de salud para que pudieran llevarlo a los países de origen y cuando sufrían esa presión para que las niñas fueran mutiladas

documentos explicando sobre todo además como se explica kaplan con muchos sellos y muchas cintas y muchos adornos porque claro la mayor parte de las personas

pero explicándoles que era ilegal en españa y que por tanto no la podían realizar y eso ha sido una vía de escape porque como digo

y casi la mitad de las personas provenientes de estas etnias están dispuestas

lo que necesitaban era una protección cara a la presión social que sufrían sus países de origen y vemos como el departamento de salud ha puesto esto en marcha y en las noticias que leemos

leo literalmente es de emakunde el departamento de educación en el

y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo tiene como uno de sus tres objetivos estratégicos poner en marcha mecanismos para la prevención

y respuesta eficaz de la violencia de género implicando de manera especial a toda la comunidad educativa muy bien y es cierto que en

en el año dos mil tres la mutilación genital femenina se introdujo en el código penal me parece que es el ciento cuarenta y nueve punto dos

metiendo la mutilación genital femenina como una forma de violencia contra las mujeres entonces por qué estamos hoy aquí y sobre todo por qué

interpelamos a la señora consejera pues queremos interpelarle sin ninguna agresividad y sin ningún reproche pero sí queremos pedirle algo

nosotros consideramos que es el departamento de educación el que debiera liderar

genital femenina y por qué lo consideramos así pues porque las potenciales víctimas el espacio donde se encuentran en el que son conocidas en el día a día es en los centros educativos el departamento de salud puede hacer

desde el punto de vista preventivo mucho menor porque puede ser que esas niñas no pasen por un

los centros de salud y el departamento de sanidad no se entera y a la vuelta de los países o también se está empezando a practicar entre nosotros cuando se ha practicado sí lo detectan cierto pero es

y aquí de lo que intentamos no es remediar una mutilación lo que intentamos es

prevenirla y quién conoce mejor que nadie a las potenciales víctimas

a sus padres dónde se puede intentar concienciar dónde se pueden ofrecer esa firma de documentos que

a la presión que van a sufrir en sus países de origen para que lleven a cabo esta

pues el mejor sitio es en los centros educativos y yo lo siento porque me dirá la señora consejera

pues me temo que sí me temo que sí pero además nosotros lo planteamos como un esfuerzo interdepartamental porque desde luego

donde más se puede hacer es en los centros educativos pero también habrá otros departamentos que tienen que intervenir por supuesto el de salud que parece que es el que ha avanzado protocolos más elaborados pero claro es que el departamento de salud probablemente se entere

ya efectuada tendrá que intervenir el departamento de justicia por supuesto tiene que intervenir la lehendakaritza a través

y probablemente los mismos jueces necesitarán puestas al día de un fenómeno que es no nuevo pero

pero nosotros lo traemos como interpelación a la consejera de educación para la labor preventiva y donde mejor la podemos realizar para esas

por los índices constatados porcentualmente de crecimiento pues donde mejor vamos a poder realizar esa labor preventiva como decía es en los centros de enseñanza y eso es lo que queríamos pedirle hoy a la consejera

izaera unibertsalekoa eta munduko herrialde guztietan eragina duen ardura legez la agenda dos mil treinta supone un avance sustancial desde una perspectiva de género ya que por un lado se recoge como un objetivo específico objetivo cinco

y por otro lado la igualdad de género y el empoderamiento de las están reconocidos como elementos fundamentales para la consecución del resto de objetivos y metas propuestas entre las metas objetivo cinco referido se recogen en su apartado tercero eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina el compromiso de los estados con este objetivo va más allá de lo formal

se lleva trabajando intensamente en estas políticas la ley cuatro barra dos mil cinco del dieciocho de febrero para la igualdad

define la violencia contra las mujeres como cualquier acto violento por razón de sexo que resulte

o psicológico o en el sufrimiento de la mujer incluyendo las amenazas de realizar tales actos

de acuerdo con el diagnóstico de mutilación genital femenina realizado por emakunde en el año dos mil catorce en la comunidad autónoma de euskadi viven alrededor de once mil personas provenientes de países en los que se practica la mutilación genital femenina

proteger a estas niñas de ser mutiladas sin alarmismo y sin descuido

sin alarmismos porque es evidente que la mayor parte de ellas no están en riesgo real de ser mutiladas debido que además del país de origen hay que considerar en cada caso concreto la etnia y otros indicadores de riesgo como son el

en relación a la mutilación genital femenina y sin descuido

estadístico es necesario estar vigilantes de hacer la valoración del riesgo concreto y real para cada niña o adolescente para poder adoptar las medidas procedentes en cada caso

pero no es la única y es necesario abordarla teniendo en cuenta todas las demás prácticas culturales tradicionales que tienen como base la desigualdad de género matrimonio infantil temprano y forzado la alimentación forzada de mujeres

los tabúes nutricionales y prácticas tradicionales relacionadas con el parto la preferencia sobre el hijo varón con todas sus implicaciones

el infanticidio de niñas los embarazos tempranos o la dote beharrezkoa da emakumeen eta nesken aurkako jardunbide kaltegarri guztiak batera eta elkarrekin lotuta ulertzea

modu askean erabiltzeko oztopo ere bada de acuerdo con lo que he comentado a lo largo de mi intervención

la principal línea de intervención debe incidir sobre todo en la prevención basada en un trabajo interdisciplinar culturalmente respetuoso en lo que a los ámbitos sanitario

en consecuencia los departamentos de educación y salud del gobierno vasco junto con emakunde vienen desarrollando desde la pasada legislatura un trabajo colaborativo que tiene como fin

fruto de este trabajo a principios del año dos mil dieciséis de manera coordinada además de la guía de actuación en el ámbito sanitario para la prevención y detección de la mutilación genital femenina guía muy reconocida

en colaboración con emakunde está vigente e implementado el protocolo de prevención de la mutilación genital femenina en el ámbito educativo

desde el departamento de educación asimismo y en el marco del plan director de coeducación de la prevención de la violencia de género en sistema educativo como usted es uno de sus tres objetivos estratégicos poner en marcha mecanismos para la prevención detección precoz y respuesta eficaz de la violencia de género implicando de manera muy especial
a toda la comunidad educativa eskerrik asko uriarte

señora consejera ha dedicado la primera parte de su posición

contarnos lo que yo por lo menos ya sabía porque créame que he estudiado bien este tema y me parece bien porque puede haber otras personas que no lo conozcan y

lo acepto pero vamos le aseguro que prácticamente lo que usted ha dicho con más extensión es

y luego al final me ha hablado de este plan que hay que no sabe usted lo que me alegro

hemos visitado bastantes centros y por qué será que los responsables de esos centros por lo menos los profesores no nos han hablado de ello nos han hablado de la marginación que sufren estas menores estas menores

a extraescolares no son apuntadas a actividades más allá de las meramente educativas luego

o sus compañeros varones en lo que es el segundo círculo

de todo eso nos han hablado de esto en concreto no quiero decir que me parece muy bien pero que creo que tendría que ser algo mucho más conocido

nos dé usted ahora explicaciones porque los profesionales no lo conocen

es cierto que no podemos victimizar es cierto que no podemos estigmatizar pero también es cierto que el secreto excesivo puede hacer que no tengan verdadera repercusión

así como hay más personas que conocen la labor

que como ya le digo interviene a posteriori respecto del otro no hemos tenido noticias

entonces si existe habrá que darlo a conocer

la mayor parte de lo que ustedes nos han presentado aquí enraíza

en ese grupo interdisciplinar para la prevención y el estudio de las prácticas tradicionales perjudiciales

de la mutilación genital femenina pero le voy a dar alguno por ejemplo por qué de aquí he sacado ese cincuenta y tres coma cinco por ciento que estaría dispuesto

a la mitad de las niñas y por qué están dispuestos a mutilar a las niñas vamos a ver

motivos pero dicen que el noventa coma tres respondió que porque lo dice la tradición ese es un buen campo a trabajar

el ochenta y cinco coma nueve por ciento porque son costumbres de cada comunidad el setenta coma ocho por ciento por respeto a la autoridad

y luego el sesenta y cuatro coma tres por ciento porque es un mandato religioso y el veintiséis coma cinco por ciento que solo en cuarto

he leído esto usted me dice que existe ese plan felicidades

que se dé a conocer porque le aseguro que los profesionales muchos de ellos no los conocen cuando

y te dicen pues me imagino que sí pero lo que podemos verdaderamente visualizar es la minusvaloración de la mujer y que por favor

bajo su amparo a esa comunidad afectada

lo que queremos es que no haya víctimas porque lo que queremos es que el departamento de educación

dos mil dieciséis está vigente implementado el protocolo de prevención de la mutilación genital femenina en el ámbito educativo este protocolo de actuación en los centros escolares contempla tres supuestos de detección y de prevención

después de la matriculación en los procesos de acogida establecida por los centros se prestará especial atención a las niñas procedentes de los países con alta prevalencia de prácticas de mutilación genital femenina para ello los centros siempre

en un marco general de protección y prevención actuarán de la siguiente manera se asegurará que en el centro haya alguna persona que tenga información y formación precisa sobre esa práctica si no fuera así la dirección del centro se pondrá en contacto con el berritzegune zonal para recabar la información pertinente

recabará la información significativa que mejor le ayude a la inclusión social y personal si la familia pertenece a una etnia prácticamente o bien se observa otros factores de riesgo se orientará a la familia para que acuda a los servicios de salud

jarduteko de hecho si se detecta previsión de viajar el centro educativo realizará las siguientes actuaciones

a pediatría para que procedan a orientarle sobre vacunaciones y otros cuidados de la salud a su vez se informará al centro de salud sobre el futuro viaje y se pondrá en conocimiento

para terminar el tercer caso a la vuelta de un viaje de país de origen si se perciben cambios

una situación de riesgo la dirección del centro se pondrá en contacto con el equipo pediátrico del centro de salud correspondiente para comunicarle la situación de la niña circunstancia esta

la dirección del centro notificará a los servicios sociales municipales el hecho para que puedan valorar la situación así como para que se pueda realizar un seguimiento coordinado con otras instituciones y servicios la operativización de este protocolo forma parte de la oferta formativa de los berritzegunes zonales

orientadores y consultores y asimismo a los seminarios de coeducación

en el segundo plan de atención al alumnado inmigrante que hacen suyas algunas de las propuestas realizadas por los distintos agentes el nuevo decreto de admisión lanzado a principios de año

oficinas territoriales de escolarización el control exhaustivo sobre los certificados de empadronamiento

con menores nuevas variables a tener en cuenta en la asignación de los profesores de refuerzo lingüístico aprobadas en la comisión técnica sobre normativa información y planificación medidas

todas ellas con el mismo objetivo principal lograr un mayor equilibrio cohesión social interculturalidad y convivencia en nuestros centros educativos

me pregunto cuál es el objeto realmente de su pregunta justamente hoy no conviene confundir

ocurrió algo muy grave porque es muy grave que se

se queme que se incendie de una manera deliberada

trataremos el asunto y de seguridad pero también de la organización sanitaria y de las relaciones laborales el acto vandálico de sabotaje destruyó el pasado doce de mayo treinta y cinco ambulancias de la empresa ambuibérica que ha asumido labores de transporte sanitario en concierto con el departamento de salud del gobierno vasco días antes

noventa ambulancias fueron atacadas también y destruidos sus neumáticos también esas empresas de otra empresa de la empresa

hemos visto otras cuestiones otras expresiones agresivas amenazantes pintadas en las empresas

la empresa adjudicataria ambuibérica en este caso ha sido una empresa que

ha recogido un encargo y un mandato del gobierno en relación con el transporte sanitario cumpliendo estrictos requisitos y desde luego que hemos visto las características en el caso del sabotaje y el hecho de que forma parte

que ocurre en una especie de conflicto laboral aunque el conflicto laboral en relación con lo que es

ha sido subrogada a la nueva empresa que se van a modificar las condiciones laborales

con la negociación y los trabajadores queremos saber desde luego cómo valora la afectación al servicio de transporte sanitario de euskadi la destrucción por sabotaje de treinta y cinco ambulancias ocurrida el pasado doce de mayo en arrigorriaga y queremos ver un poco y saber un poco las claves

cómo lo analiza desde luego el departamento de sanidad muchas gracias eskerrik asko barrio jauna darpón jauna zurea da hitza

nuestra valoración y la del gobierno vasco es de absoluta condena y repulsa ante un acto vandálico e incalificable como usted ha dicho ha ocurrido el pasado sábado día doce en el polígono industrial de arrigorriaga

como todos saben en esa fecha se produjo un sabotaje en el que fueron quemadas treinta y cinco ambulancias de la empresa que iba a comenzar a prestar el servicio de transporte programado

provocado es un acto reprobable e inconcebible que ataca a medios materiales en este caso las ambulancias con el objetivo de entorpecer e impedir la prestación de un servicio público básico para las personas el transporte sanitario

para nosotros inexplicable cuyas causas y autores a día de hoy son desconocidas

y los responsables puedan responder por los hechos acaecidos eskerrik asko darpón jauna barrio jauna zurea da hitza

sí luego le preguntaremos a la señora beltrán de heredia sobre la investigación de la policía en relación con este gravísimo suceso pero sí que nos gustaría

el señor consejero en relación con el conflicto

de la actividad de un conflicto como este puede haber nuevas expresiones porque hemos visto que han sido varias las expresiones violentas o amenazantes los avisos que se han ido

su temor o su reserva de poder realizar con normalidad el servicio eso queremos saberlo porque nos interesa mucho sabemos que es un servicio que afecta por lo que hemos podido leer dos mil servicios diarios de media realizan esas ambulancias concertadas hemos visto alguna declaración de algún afectado alguno de esos días puntuales que sufrió vamos a ver

en riesgo el servicio porque es un servicio muy importante importantísimo además que afecta a bizkaia

estabilidad laboral las empresas la decisión de las empresas de contribuir a colaborar con la sanidad

este desafío tan violento debe ser neutralizado luego nos hablarán de eso pero sí que

arreglado el asunto se ha pedido colaboración a otras comunidades autónomas

es decir conocer un poco porque en caso de que sigan habiendo este tipo de cuestiones que esperemos que no luego nos dirán si hay medidas para ello

a quien tiene que actuar en ese sentido de que nunca pueda volver a pasar muchas gracias eskerrik asko barrio jauna darpón jauna zurea da hitza

señor barrio estoy absolutamente seguro de que usted coincide conmigo en que la violencia

ni en ningún otro lo único que puedo decirle es que este hecho lamentablemente coincidió en el tiempo con el relevo entre empresas de transporte sanitario al finalizar un contrato e iniciarse otro contrato

del correspondiente concurso público por lo tanto para nosotros

el relevo entre estas empresas subrogó al cien por ciento de la plantilla todas las personas que estaban trabajando en la anterior empresa están hoy trabajando en la nueva tampoco ha supuesto ninguna modificación alguna de sus condiciones laborales

hoy las mismas condiciones laborales que tenían el mes pasado y tampoco esto ha supuesto modificación o ruptura alguna de la negociación del convenio colectivo en el que por mandato de este parlamento estamos empeñados en conseguir un convenio autonómico y la negociación del mismo continúa actualmente en marcha

en el transporte sanitario urgente y que evidentemente cumple con todos los requisitos que el gobierno vasco y el departamento de salud exigen a cualquier empresa que opta a la prestación de un servicio público soy consciente de que este tipo de actos suponen para todas las partes afectadas

y apoyo al conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector del transporte sanitario y a la empresa afectada

los primeros días hemos tenido afectaciones del servicio que afortunadamente se han ido solucionando

en este problema como en otros que me ha planteado usted a lo largo de la legislatura pasada algunas múltiples veces haremos lo que acostumbramos resolverlo

en el año dos mil once han sido objeto de negociación colectiva en la mesa sectorial en múltiples reuniones desde el año dos mil catorce sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo

y hasta la fecha no ha habido una única resolución judicial finalizando el proceso hubo una sentencia el año pasado en primera instancia que parece usted haber olvidado

al reconocimiento de los niveles de desarrollo profesional cuestión que ya

pero no a la percepción retributiva ya ha habido una segunda sentencia la que parece que usted

como consecuencia de un recurso que reconoce también la percepción retributiva pero que puede ser recurrido en casación el tema no es baladí nos enfrentamos a una cuantía económica de alrededor de cien millónes de euros que no afecta al conjunto de la plantilla de osakidetza sino a menos de un tercio de la misma

y por último pero no menos importante porque entendemos que una decisión así debe ser objeto de negociación en la mesa sectorial y para nosotros ahí está la clave señora ubera

el departamento de salud resolverá las convocatorias de desarrollo profesional

y tampoco dude el gobierno vasco siempre cumple las sentencias judiciales eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

siempre siempre no tenemos el tema de treinta y cinco horas

me puede usted dar la propuesta en mano que seguro que las estudiaré

ha dicho usted en el turno primero que no le gustaba cómo estaba conceptuado es fruto de negociación colectiva y así se aprobó tal y como está en la mesa sectorial

volveremos a llevar a la mesa sectorial las alternativas que pueden dar cumplimiento sentencia o las que resulten de si finalmente ponemos el recurso y además llevaremos también la posibilidad de una nueva convocatoria de desarrollo profesional

público porque si bien ahora recientemente

la resolución de las convocatorias de desarrollo profesional en dos mil once no estaba tan interesado dado que las convocatorias recurridas derivan de un pacto suscrito en la mesa sectorial

consideramos que tanto el recurso o las fórmulas que puedan darse para el cumplimiento de la sentencia

dentro del ámbito de la negociación colectiva así pues

y al entendimiento para resolver la carrera profesional pero lo vamos a hacer en el foro legitimado para ello que no es otro que la mesa sectorial de sanidad karrera profesionalari

egin dezagun dagokion foroan foro egokian osasun arloko mahai sektorialean a veces cuando le escucho

soy modista pero no eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

bien hilamos con la pregunta anterior hablamos de la gravedad de unos hechos con varias dimensiones desde luego está la sanitaria y la laboral bueno algo hemos hablado antes con el señor consejero y está es la de seguridad y la de orden público no parece que

no hay o no debía de haber explicaciones laborales pero debe

cuál es el origen de este sabotaje desde luego las consecuencias y qué investigación

hemos visto sabotaje intimidación es posible que hasta un terrorismo con facciones

vuelvo a decirlo porque estos sabotajes empiezan por ahí y además van en fase porque ha habido amenazas ha habido pintadas ha habido de hecho y luego sabotajes más graves quemando además con delito ecológico porque se queman neumáticos coches gasolina

en ese sentido ahí está la cuestión es muy grave pero sí que queremos saber desde luego

cómo se están abordando con qué criterios el departamento de seguridad del gobierno vasco la investigación de los referidos hechos de sabotaje qué información nos puede dar y

afectadas hay una empresa o dos empresas a las que se dirigen algunos ataques y

amenazados cómo lo valora señora consejera

ambulancias calcinadas y sobre todo sobre la actuación policial lo que le tengo que decir sobre todo es que la investigación está abierta que sigue avanzando que se han planteado todas las hipótesis desde luego no barajamos

panorama tan catastrófico como el que usted nos ha dibujado aquí se han planteado como digo distintas hipótesis para ir acotando para ir descartando unas e intensificando la línea de investigación

se han analizado todas las evidencias recogidas en el lugar de los hechos aquellas que recogieron los servicios de inspecciones oculares y estamos a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio se han recogido también parte de esas evidencias a través de las imágenes

obtener esas imágenes cenitales se están analizando esas imágenes y también las que han captado otras cámaras del polígono también se analizan todos los testimonios recogidos se efectúan los análisis de laboratorio como le he comentado antes sobre las evidencias que se han recogido

delictivos precedentes que han afectado a servicios similares en euskadi es decir a servicios de ambulancias en euskadi con el mismo fin también para tener referencias

y en concreto el incendio que afectó a esta misma empresa ambuibérica en ciudad real en enero del dos mil trece este tipo de investigaciones como cualquier otra

lógicamente de mucha prudencia de mucha discreción requiere ser exquisitos en la observación de las garantías técnicas y legales por lo que cualquier especulación ajena a la propia investigación no nos va a conducir a nada corremos sin embargo el riesgo de generar

incertidumbre por eso comprenda usted que haga un llamamiento a la prudencia al rigor y sobre todo a la confianza en los servicios de investigación de la división de investigación criminal y policía judicial de la ertzaintza eskerrik asko

en otras partes de españa ataques también a empresas de ambulancia en relación con determinados conflictos y desde luego nosotros la prudencia

la investigadoras y la confianza desde luego en quienes están llevando a cabo las investigaciones

comentábamos antes el conflicto digo el que se ha materializado

en su momento en abril luego ha habido otro sabotaje a la

de noventa vehículos en sus ruedas y después

en ese mismo sabotaje de la semana anterior había habido otras pintadas advirtiendo de un segundo aviso es decir luego ha llegado lo que ha llegado es decir no sé en el análisis que puede hacer usted si sospechan o si piensas o si se piensa que esto puedo seguir es decir

estos actos vandálicos temen ustedes que puedan tener continuidad y si temen ustedes que

qué medidas están tomando estamos hablando de una empresa estamos hablando de que se actúa violentamente contra esta empresa o estas empresas que

que pueden afectar a personas a sanitarios a conductores conductoras a pacientes es decir en relación con el tema no sé si en ese sentido no es

que hay unos hechos una relación de hechos que se han materializado con violencia y la percepción el análisis su ámbito de conocimiento de si eso puede seguir ocurriendo si se temen

esa es una hipótesis que está sobre la mesa de investigación y se están dando todos los pasos técnicos y legales necesarios para esclarecer el origen del fuego

de bilbao quien en su caso podrá autorizar la realización de nuevas pruebas

es que esperemos a que las investigaciones concluyan que los resultados se trasladen al juzgado correspondiente por tanto insisto prudencia

confianza plena en los servicios de investigación de la división criminal y policía

estos hechos de la quema de las treinta y cinco ambulancias eskerrik asko eskerrik asko

ese te hiru elkartearen leean izandako

buenos días a todas señora consejera queremos preguntarle hoy por la actuación de su departamento en diferentes procesos abiertos en ede taldea y

como sabrá ede taldea es un grupo de entidades dedicado a intervención social en bizkaia y euskadi dentro de las cuales se encuentra

una asociación que realiza tareas de informática y diseño fundamentalmente recientemente ede taldea ha decidido de forma unilateral

a concurso de acreedores para despedir a toda su plantilla

y que sea fogasa quien pague tal y como denuncian los sindicatos y a pesar

beneficios actualmente la plantilla se encuentra en huelga indefinida desde el veintiuno de febrero de este año en oposición a los despidos y solicitando

en las entidades del grupo en los últimos años se han producido varias irregularidades laborales denunciadas a la inspección de trabajo y algunas como esta con sentencia judicial

es el departamento que usted preside del que depende directamente inspección de trabajo por ello nos gustaría preguntarle qué actuaciones ha tomado el departamento de trabajo y justicia a través de inspección de trabajo en torno a esta cuestión y qué medidas plantea llevas a cabo mila esker

eguerdi on guztioi señora garcía me pregunta sobre qué actuaciones ha tomado mi departamento a través de la inspección de trabajo en el caso de la empresa ese te tres elkartea

en primer lugar tengo que decirle lo que ya he respondido por escrito a algún miembro de su grupo parlamentario

legal de dar información concreta y precisa sobre las actuaciones emprendidas por la inspección de trabajo y seguridad social ya que su ley ordenadora establece el carácter secreto de ellas no obstante voy a contestarle desde la competencia que como autoridad laboral tiene el departamento

la huelga con carácter indefinido fue convocada por la plantilla reunida en asamblea y fue presentada en la delegación de trabajo de bizkaia el quince de febrero de dos mil dieciocho en primer lugar estudiamos con el fin

o no de dictar servicios mínimos si se debía considerar que esta empresa prestaba un servicio que pudiera considerarse esencial para la comunidad deduciendo que no la empresa pertenece al grupo ede grupo vinculado con la intervención social pero es una entidad que desarrolla servicios tecnológicos y

a necesidades tecnológicas y de comunicación durante el tiempo que dura la huelga y hasta el día de hoy no se ha iniciado en la delegación de trabajo de bizkaia ningún expediente sancionador por actos que pudieran ser considerados contrarios al derecho de huelga

infracciones en el orden laboral no dude señora garcía de que estas investigaciones se van a realizar de forma rigurosa y si de ellas se deduce alguna infracción se iniciará el correspondiente expediente sancionador por otra parte usted hace referencia a que la empresa

se encuentra incursa en un procedimiento a regulación de empleo a día de hoy

puedo decirle que el juzgado de lo mercantil número dos de bilbao

de trece de enero de dos mil dieciocho anunció que por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete se declaraba el concurso voluntario al deudor

elkartea por lo tanto dado que la empresa está inmersa en un concurso de acreedores es el juzgado de lo mercantil el competente para intervenir sobre los expedientes de regulación de empleo que pudieran presentarse

del juzgado en orden a elaborar el informe que prevé el artículo sesenta y cuatro de la ley concursal en caso de que el administrador

si esto se produjera el departamento tanto la autoridad laboral como la inspección investigará y actuará de forma rigurosa para dar cumplimiento a dicha petición en años anteriores han tramitado en la delegación de trabajo de bizkaia varios expedientes tanto de inaplicación de convenios colectivos como otros expedientes de regulación de empleo

todos ellos están ya terminados y archivados y entiendo por lo tanto que no son objeto de su pregunta eskerrik asko

porque no me ha respondido a nada de lo que le he preguntado voy a intentar volver a explicárselo las trabajadoras y sindicatos presentes en ede taldea y ese te tres elkartea

en varias ocasiones la política laboral que se sigue en estas entidades

en dos mil quince y años posteriores como usted lo oye hace tres años señora san josé pero no es solo esto el veintidós de febrero

las trabajadoras y sindicatos interpusieron denuncia a inspección de trabajo

no apareció por la empresa ni mandó a nadie para constatar los hechos y poner freno a esta vulneración constitucional ni a la inspección de guardia como es su obligación ni a ninguna otra

tendrá su departamento digo yo que es quien gestiona el servicio de inspección de trabajo en la inacción demostrada en este caso no pueden seguir ustedes mirando hacia otro lado mientras se vulneran los derechos laborales de las trabajadoras de estas empresas

pueda cumplir sus funciones es responsabilidad del departamento de trabajo y justicia dotarla de los suficientes recursos y medios para que pueda velar por el cumplimiento de unas condiciones laborales

sigo los sindicatos interpusieron demanda por sustitución ilegal de huelguistas y pos derivar trabajo

a otras empresas el pasado cinco de marzo y después de celebrarse el juicio en sentencia del pasado tres de mayo se condena a ede taldea a cesar inmediatamente la vulneración del derecho fundamental de huelga y pagar solidariamente una indemnización de doce mil euros la inspección de trabajo ni está ni se le espera

ni después de la sentencia el jueves pasado el diecisiete de mayo

porque el grupo sigue vulnerando el derecho de huelga pese a la sentencia la inspección de trabajo aparece nos puede explicar qué está pasando y qué está haciendo su departamento con respecto a esta situación esa es mi pregunta porque nosotras entendemos que la supervisión de la labor que tiene que realizar inspección de trabajo depende directamente de su departamento y por tanto también es su responsabilidad y tienen que asumirla

sigue sin ponerse en contacto con las representantes del comité de huelga
además en lo que respecta a concurso de acreedores de esta asociación que forma parte de un grupo laboral de empresas eskerrik asko garcía anderea amaitu zaizu denbora

señora garcía creo que la que no me ha escuchado es usted cuando le digo que las actuaciones de la inspección de trabajo son reservadas y de hecho

y creo que no debemos de actuar con injerencias en la inspección de nuestras intervenciones se deduce desde luego una situación yo creo que complicada que está afectando a los trabajadores y trabajadoras

y desde luego su futuro desde el punto de vista legal está en manos del administrador concursal y del juez del concurso

la actividad y puedan mantenerse los empleos no obstante sí que quiero manifestar la disposición del departamento a mediar con el objetivo desde luego de mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras siempre que nos soliciten esa mediación eskerrik asko